publikoa egiten eta literalki esaten este inicio de curso

eta eragile ezberdinekin hitz egiteko pero no se ha querido dar la vuelta

baja pero que es un dato que no aguanta un mínimo contraste con decenas y decenas de aulas en nuestro territorio por tanto apoyamos esa propuesta

sola no puede lo hemos dicho muchas veces no puede asumir la carga de acabar con la desigualdad social pero es imprescindible para la igualdad y la justicia social

por qué a muchas escuelas los epi siguen llegando a cuentagotas como ha explicado ahora ikoitz arrese

bloqueo de la cadena de suministros global y sigue pasando zergatik ez zen

disfrutando de su derecho a las vacaciones pero es que lo que hay que decir es que las últimas semanas

trabajando y miles de directores y directoras de la escuela pública hezkuntza komunitateak

estamos hoy aquí para hablar un poquito de lo que es la educación y exponer todos los problemas que vemos la pandemia nos ha dejado un panorama desolador en el ámbito educativo

son varios de naturaleza diversa y con distintos alcances tenemos que distinguir varios momentos a la hora de hablar de un estado de la cuestión sobre la educación en el país vasco

cuál era la situación de la pandemia son por todos conocidos los problemas que se venían arrastrando y que se han multiplicado exponencialmente haciendo que nuestro sistema educativo literalmente se tambalee ante nuestros ojos y son testigos directos de esta afirmación los docentes

el nivel educativo ha bajado la metodología no se ha adaptado correctamente no se han garantizado los espacios que salvaguardan la seguridad de los trabajadores y no se ha pensado nos dirigimos en este caso al departamento de educación

esto es qué hacer cuando en un aula se cierra porque da un positivo es prudente mandar a los niños a casa con los abuelos siendo la población de más riesgo en esta pandemia

hablemos de tiempos de la pandemia entendemos que el inicio y su desarrollo durante el tercer trimestre del curso escolar todos estos problemas emergencias sanitarias en realidad

en el modo y forma correspondiente estamos aquí para hacer una oposición responsable ahora bien de marzo a septiembre hay seis meses medio año es el tiempo que han tenido para dar cuenta de esas emergencias y tratar de solucionarlas pero qué nos hemos encontrado un plan de vuelta al cole totalmente vertical obviando las necesidades educativas que solicitaba la comunidad un ejemplo de rabiosa actualidad la obcecada decisión del gobierno vasco

zanja la disputa con el único alegato de que no es viable para los padres déjennos a los padres decidir lo que es viable o no para nuestras familias escuchen

no somos menores de edad no nos traten como tal pero esto no es lo único porque también hay un argumento anticovid a favor de la jornada continua

no será mejor dos aglomeraciones diarias que cuatro ustedes se creen en la posesión de la verdad absoluta y no escuchan a nadie por eso tienen pancartas en los colegios por eso los padres se quejan y por eso los trabajadores luchan desde vox creemos en la educación como un ascensor social

no juegan con las mismas cartas los hijos nacidos en familias vascoparlantes que las castellanoparlantes

para ustedes por lo que estoy viendo lo más importante es el euskera el euskera y el euskera asunto que nos llama poderosamente la atención porque hablan de euskera pero no de literatura

pero la historia no aparece por ningún lado y eso no nos sorprende pero es el hecho que corrobora su obsesión con el euskera que para ustedes la educación es simple y llanamente adoctrinamiento no quieren que nuestros hijos recuperen todo el conocimiento que objetivamente han perdido durante estos últimos meses

creemos que la solución pasa por la igualdad y la solidaridad entre los cuarenta y seis millónes de españoles con una competencia única como dice
rousseau lo aparece además escrito en el emilio la única costumbre amaitu mesedez que hay que enseñar a los niños

seguramente el tema más importante y en el que nos jugamos el futuro de euskadi y de españa y posiblemente en el que peor desempeño hemos tenido los políticos

a la vez que el desempeño demostrado por los alumnos

hoy lo que nos trae aquí es una propuesta sobre la adopción de medidas de urgencia para el sistema educativo como consecuencia del covid me hubiera gustado un debate de más alcance

pero entiendo la urgencia de esta situación y espero que el resto de problemas del sistema educativo vasco los podamos abordar con la profundidad necesaria

haya quedado superada por la situación y buena parte de ella ya no tenga sentido porque a estas alturas del curso

pero seguro que estamos de acuerdo en tres puntos porque sí que hemos percibido durante este tiempo una clara voluntad de acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios y me alegra mucho por ello porque estamos ante un tema que verdaderamente lo merece

y en particular en tres uno en que necesitamos más profesores y personal no docente en nuestras escuelas

por ejemplo los profesores que están inscritos en las listas de sustituciones la consejería como ya ha dicho algún

la contratación de mil profesionales de refuerzo de este compromiso de importancia crucial para todos seguimos sin noticias hasta hoy espero que el señor consejero

o reconozca que no debemos de seguir esperando también estoy seguro de que estamos de acuerdo

espacios e infraestructuras ya que hemos aprendido que las actuales instalaciones no se adecúan a las necesidades de una situación como la que estamos viviendo hoy en día

pero creemos que ahora mismo resulta imprescindible y por último aunque es el punto más importante

en que el alumno debe ser el centro del sistema educativo por lo que no se puede aceptar que haya alumnos de primera o de segunda

ya sea concertado o público recuerdo a todos que la educación concertada y la especial también son públicas y por lo tanto cualquier medida que implantemos debe afectar a toda la red de educación vasca independientemente

como algunos de ustedes saben me dedico a la docencia universitaria desde hace más de treinta y cinco años y les puedo contar mi experiencia durante la crisis del covid en marzo a todos

en un tiempo récord tuvimos que reprogramar todas las asignaturas ajustar los contenidos cambiar las metodologías reevaluar o cambiar los sistemas de evaluación reuniones y clases que eran presenciales se convirtieron en virtuales etcétera

y una sobrecarga importante para todos para alumnos para centros y para profesores pero lo hicimos y gracias a ello pudimos terminar el curso de aquella manera

que era un objetivo muy importante pero en este tiempo hemos comprobado algo que ya sospechábamos

a día de hoy tiene un nivel de calidad

y una de las razones se puede hacer un diagnóstico más completo porque hay muchas más pero una de ellas es que no disponemos de la infraestructura necesaria ni en los hogares

suficiente para dotar a docentes centros y alumnos de redes de comunicaciones de hardware de software actualizado de formación en tecnología y que esto lo hagamos lo antes posible ya sé que han salido últimamente ayudas para los hogares pero

se trata de hacer mucho más cuando acabó el curso y la primera ola de la pandemia se relajó

o al menos la parte más gorda y no aprovechamos el tiempo para reparar la segunda ola que todos los expertos nos decían que llegaría y llegó antes de lo esperado

como se pudo hemos iniciado el curso otra vez como podemos improvisando sin recursos suficientes sin ideas claras y dando bandazos

ha publicado el protocolo de actuación en los comedores escolares el veintidós de septiembre quince días después del inicio del curso

esta es la buena gestión con la que nos suele engañar continuamente el gobierno

perdón no será que por esto y por algunos otros pequeños detalles ha decidido el lehendakari sustituir a la consejera de educación

implícitamente una gestión lenta ineficaz e incompetente que luego ha compensado sorprendentemente con una rápida incorporación

ahora mismo tenemos ya aulas cerradas profesores contagiados

y por tanto cursos interrumpidos nada más empezar programas docentes comprometidos y ya veremos qué pasa en cuanto llegue la época de las primeras evaluaciones

así que necesitamos con urgencia cribados masivos y frecuentes

fiables y baratos podrían ser una buena alternativa que habría que valorar por eso en las escuelas en los colegios y en las universidades

hay miedo y confusión porque las medidas adoptadas no son suficientes no son claras ni mucho menos homogéneas ni están basadas en la evidencia científica ni llegan a tiempo desde aquí animamos al nuevo consejero de educación a tomarse ahora sí el tema en serio

y eso implica entre otras cosas contar con un consejo científico asesor relevante

proporcionar los recursos necesarios un mayor nivel de información y trasparencia

en suma a actuar con valentía anticipándose a los acontecimientos y liderar la respuesta que necesita la sociedad situación que hasta el día de hoy desgraciadamente

que sí que consideramos que ayudaría a mejorar la situación en los centros educativos y es la figura del enfermero escolar enfermero enfermera escolar no podemos pedir como estamos haciendo actualmente que haya una figura de coordinador de covid en los centros

sin la formación sanitaria adecuada esta pandemia ha demostrado que el sistema educativo tiene un déficit en la atención temprana tanto de alumnos como del resto de personal

podría ayudar a solucionarlo además puede ser una figura clave si la involucramos en la formación de temas sanitarios creemos que la utilidad de esta figura por tanto está más que acreditada y por ello trabajaremos de forma decidida

para terminar quiero reiterar desde aquí nuestro reconocimiento y apoyo a todos los profesionales de la docencia que han hecho un esfuerzo ímprobo para adaptarse a la nueva

con el objetivo de sacar adelante el curso pese a las circunstancias vaya desde aquí nuestro agradecimiento y nuestro apoyo por su esfuerzo y su dedicación nunca suficientemente compensada han demostrado que el futuro de este país
está en buenas manos gracias a todos ellos eskerrik asko gil jauna

bien buenos días pues empezamos como era de prever la pandemia la maldita pandemia nos ha cambiado la vida a todos no es un tema

es algo que afecta a nivel mundial y al que por desgracia no hemos sido capaces de afrontarlo con unos parámetros comunes

a la educación la educación como no podía ser de otra manera junto con la sanidad es una prioridad de este gobierno

es para evidenciar que la educación pública y la sanidad pública son elementos troncales en cualquier sociedad decente que se quiera llamar sociedad avanzada son servicios esenciales que han conseguido sostener y no dejar caer

sin una sanidad pública que ha dado lo mejor que tenía de sí y sin una educación pública que ha sostenido a nuestras familias y a nuestros alumnos son servicios por tanto

servicios que hay que adecuar a la grave situación que nos ha dejado esta pandemia y eso es algo a lo que todos estamos entregados y digo todos porque sí quiero

se han dado en la tribuna y es algo que en un tema como la educación

es absolutamente fundamental que las soluciones y las propuestas que se hagan en el tema educativo se hagan con el mayor consenso posible

que todos tenemos que dejar pelos en la gatera para dar lugar a ese espacio común en el que nos podemos encontrar es verdad que cada uno de acuerdo con un cristal distinto y está en su derecho de hacerlo pero creo que si queremos ser objetivos los datos ahora mismo nos dicen que la situación

de forma satisfactoria de la mejor forma posible no seguro que no seguro que existen fallos como tienen que existir lógicamente en una situación absolutamente anómala que nos ha cogido a todos absolutamente desprevenidos pero contra lo que algunos agoreros

la reincorporación se ha llevado a cabo de forma escalonada

se ha producido con normalidad con la normalidad que podía esperarse con una situación de pandemia y no era precisamente una situación sencilla la que se abordaba hablamos de ochenta y dos mil alumnos de infantil y preescolar de ciento treinta mil en primaria cerca de noventa mil en secundaria

de bachillerato por eso quiero sumarme al reconocimiento al esfuerzo que toda la comunidad educativa ha hecho para hacer posible

de la mejor manera posible se han producido contagios es cierto se han producido algunos contagios en el ámbito escolar ha habido más positivos pero lo han sido en la mayoría de los casos por contagios en el seno familiar que se hubieran producido de todas formas estuviera abierta o no la escuela y ha habido aulas que ha habido que cerrar es verdad afortunadamente no demasiadas sigue siendo un porcentaje pequeño y muy pocos centros han tenido que cerrar en su totalidad en total las aulas que han cerrado constituyen como digo un porcentaje pequeño de las aulas que existen en euskadi

que quiero reiterar siguen siendo mayoritariamente no por contagios en la escuela sino por contagios familiares se están tomando medidas para seguir garantizando una educación de calidad

se ha hecho referencia ya aquí pero el gobierno ya ha previsto la contratación adicional

para reforzar la plantilla en los centros con mayor número

también se ha anunciado la contratación de personal para reforzar el servicio de comedores escolares y eso a pesar de que somos afortunadamente la comunidad autónoma con menor ratio de alumnos por aula y creo que eso facilita las cosas eso significa que tenemos que conformarnos

por rebajar los ratios porque en algunos casos físicamente es imposible establecer las distancias suficientes dado el tamaño de algunas aulas

se han adquirido veinticuatro mil trescientos sesenta y uno equipos portátiles para ponerlos a disposición de los centros educativos tanto para el alumnado como para el profesorado

se ha incrementado el servicio de limpieza con las empresas adjudicatarias y todos los meses se envía a los centros escolares

creo que se ha hecho mención a ese aspecto pero se hacen envíos

lo que está claro es que nos guste o no durante un tiempo no sabemos desgraciadamente cuánto

confinamiento el cierre de escuelas fue una medida excepcional

los transportes el trabajo presencial los bares las piscinas el ocio las escuelas es lo último que ha abierto

otras como asturias ha preferido esperar hasta hace escasamente unos días en función de lo que ellos han determinado que era la situación de cada comunidad pero en cualquier caso ni en este tema ni en el de los transportes ni en el del trabajo ni las relaciones familiares

no existe el riesgo cero no va a existir nunca es imposible y eso es algo que tenemos que tener en cuenta seguirá habiendo riesgos por desgracia

y habrá que enfrentarse a ellos tendremos que ponerles coto de la mejor manera posible sin renunciar a que las escuelas sigan funcionando porque es algo con lo que hay que convivir no podemos renunciar a la educación presencial es fundamental para nuestros jóvenes el representante de ciudadanos lo decía la educación a distancia puede estar muy bien pero nunca va a poder sustituir a la presencial

y quiero poner aquí el valor también de la propuesta que han hecho la mayoría de los ayuntamientos muchos de ellos por ofrecer locales alternativos para complementar los centros escolares

hecha desde el conocimiento del día a día de sus municipios porque en muchos casos podrá ayudar a reforzar carencias que desde el punto de vista estructural tenemos en este caso no y quiero hacer desde aquí una reflexión

porque probablemente haya que tener en cuenta nuevos parámetros nuevas necesidades nuevas actuaciones que desde luego no estaban en la mente

la situación que ahora tenemos y ahora estamos en el momento oportuno para hacerlo en todo caso reitero los socialistas apostamos firmemente por la educación presencial la educación es algo más que adquirir conocimiento los valores las habilidades sociales y las destrezas

puntualmente la presencia en los centros puede no ser posible es verdad y hay que tenerlo en cuenta y para esos casos habrá que buscar

ya recoge el firme compromiso de desarrollar un plan de escuela digital

y proveerá apoyos específicos a los menores más vulnerables los socialistas lo hemos defendido siempre y lo hemos hecho también en la negociación del acuerdo de gobierno que da sostén a este gobierno nuestro programa recogía como ya he dicho la elaboración de un plan de inversiones tecnológicas en centros educativos que permita

la modernización tecnológica la digitalización de las aulas

en la educación dotando especialmente a los alumnos carentes de recursos que los hay evidentemente de los medios necesarios para poder continuar con una formación no presencial en caso de que sea necesario y a largo plazo el acuerdo de gobierno prevé también y me parece

un gran acuerdo entre las distintas formaciones políticas y agentes educativos para aprobar una ley vasca de educación que dé respuesta a los retos de futuro de nuestro sistema educativo

que reconozca y promueva el papel esencial de la escuela pública y su carácter laico así como la igualdad de oportunidades para el aprendizaje en todas las enseñanzas e insisto que se hará desde el diálogo con todos los partidos políticos y con los protagonistas del ámbito educativo y aquí quiero poner en valor la actitud del consejero de educación

a las aulas y lo afrontó con diálogo y reuniéndose con los agentes educativos estoy seguro de que esa va a ser la actitud del consejero en los próximos meses de la que también hablamos en enmienda que presentamos junto con el partido nacionalista vasco y por lo tanto en esa intención de

su posición dejar claros sus perfiles pero también es cierto que todos han dejado caer una oferta de diálogo y de colaboración yo quiero recoger ese guante y comprometerme a hacer todo lo posible para que ese esfuerzo de diálogo y de consenso que hemos visto hoy en todas las intervenciones seamos capaces de plasmarlo
para afrontar los retos que nos esperan en los próximos años que no van a ser pocos precisamente eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak

ezarri dira el departamento de educación está manteniendo un diálogo permanente con la comunidad educativa desde que el pasado mes de junio

y el documento de medidas de prevención de riesgos laborales en los centros escolares de euskadi ante el riesgo de exposición al covid diecinueve elaborado por el servicio de prevención

del veintiocho de agosto fueron revisadas las actuaciones ya recogidas en dicho protocolo de adecuar las fechas de inicio de las diferentes etapas educativas así como identificar los refuerzos destinados a los centros euskal herria bilduk aurkezturiko

talde horiek la comisión de seguimiento de incidencias se reúne

un compromiso claro de adecuación y aclaración de los protocolos vigentes se ha puesto en marcha una estrategia de reuniones con todas las direcciones de los centros escolares se publica diariamente el boletín epidemiológico actualizado de situación en los centros educativos durante esta última semana la pandemia de covid diecinueve atraviesa en euskadi

estabilización y se refleja en la disminución día a día de los ingresos hospitalarios y

de la tasa de incidencia entre los escolares de tres a dieciséis años el coordinador del programa de vigilancia y control del departamento de salud de osakidetza ignacio garitano destacaba hace pocos días

cinco por ciento desde hace quince días y que en el caso concreto de los colegios se ha observado en las últimas semanas un descenso constante en la tasa de incidencia que en este momento se concreta en ciento treinta y cuatro casos por cien mil habitantes entre los vascos de tres a dieciséis años vascos y vascas de tres a dieciséis años los últimos datos

nos dicen que no hay ningún centro con actividad educativa presencial suspendida y que hay un total de ciento ochenta y dos aulas clausuradas en ciento treinta y dos

que manejamos en este curso veinte veintiuno el sistema educativo vasco cuenta con un total de diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro aulas

de ese total el esfuerzo que se está realizando por parte del conjunto de la sociedad y más concretamente por parte del ámbito educativo está contribuyendo

irakurtzen dudalako prentsan que el pnv se felicita por su gestión en el inicio del curso escolar y rechaza las críticas de bildu barakaldon

se concentran en barakaldo para reclamar más seguridad en la vuelta a clase y

había puntos suficientes de acuerdo entre su texto y la transacción es una pena que no hayan querido firmar y también no

muchas de las afirmaciones que ha hecho el señor pastor incluso algunas de las que la señora arrizabalaga también ha mencionado y lo decía al principio esta situación es tremendamente complicada para todo el mundo nada es infalible y no estamos diciendo

que esto fuera así y coincido con el señor pastor

en eso y en los temas que usted ha planteado seguramente tengamos puntos de acuerdo y puntos de desacuerdo

al acuerdo de bases creo que está lejos de esas intenciones y el tema de digitalización yo creo que tenemos un reto porque no solo es que también el ordenador y

aprovecho además y no solo es un reto del señor arriola estamos hablando también de vivienda no es lo mismo

para cada chaval y que pueda estudiar de una forma un poco más cómoda que una casa de cuarenta y cinco metros cuadrados donde viva una familia de cinco o seis personas

mucho más allá y decía

de acuerdo pero vamos a repasar ni una sola reunión lo que es trabajar para unos y para otros de cara al gobierno ni una sola reunión con la representación sindical si no me equivoco desde finales de mayo

ni una ni una sola de ningún ámbito laboral en educación hasta la reunión primera de cortesía y lo vuelvo a agradecer pero tampoco vamos a dimensionar

del nuevo consejero pero no vamos a dimensionar que es de momento una sola reunión y parece ser que la semana que viene serán otras pero

del anterior ni una sola reunión si no me equivoco desde el mes de mayo con los trabajadores y las trabajadoras de la escuela pública ni una sola creo que eso

por eso el curso ha comenzado y nos alegramos de que el índice de contagios sea muy pequeño evidentemente yo creo que eso es el consenso que tenemos todos y todas

ocupación de la vía pública que es una palabra y una acción preciosa en bilbao porque no hay un comedor en marcha en la escuela de atxuri y han tenido que pues con la imaginación ocupar esa calle para reivindicar el comedor escolar y eso no es normalidad ni nueva normalidad eso es un déficit estructural del sistema educativo

porque viene de gobernar durante muchos años y me parece creo que bueno todos podemos cometer errores pero creo que la acusación que ha realizado con la ruptura de las burbujas creo que ha estado un tanto fuera de lugar les recuerdo

matraca al principio de la pandemia y que decía que las manifestaciones eran el principio de la expansión del virus creo que si ha habido alguien responsable

han sido las familias ha sido el profesorado y han sido los sindicatos y yo estuve en esa manifestación

de seguridad como por ejemplo aquí pues estamos con bastantes limitaciones por tanto no deslicemos palabras afirmaciones que pueden ser

y también y especialmente diría por la parte de la comunidad educativa y del profesorado eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

dizuegu duela gutxi casanova jaunarekin tertulia batean partekatzen berak esaten zuen para llegar a acuerdos

muchas gracias presidenta mis primeras palabras van a ser

alberto sololuze ellos son los principales damnificados de esta catástrofe

el caso zaldibar no es más que un cúmulo de despropósitos

de establecer responsabilidades la verdad es que alguna idea tengo la tenemos todos allá cada uno con su conciencia

butaca como hizo en aquel momento quedándose varios días

todo lo que todos ya sabemos verdad señorías basta recordar que algo huele mal cuando sabemos que

una de las peores calificaciones en su última inspección y no seré la única en decir que me parece raro raro que se tardaron más de seis meses en abrir expediente al verdad pues bien este terreno tan pantanoso

teniendo en cuenta que este tema ya está judicializado habrá varias materias sobre las que se pronuncien los jueces sin embargo el día cuatro de septiembre el departamento de medio ambiente recibía la auditoría de la autorización ambiental integrada del vertedero de zaldívar y leída detenidamente

obtuvo permiso para manipular materiales de construcción con amianto pero parece que al gobierno se le pasó por alto esta autorización y que momentos

algo de lo que alguien alguna vez debería responder también concluye el informe que la evidencia disponible indica que el funcionamiento de verter reciclyng

a las condiciones de la autorización ambiental integrada del vertedero se deterioró a lo largo del año dos mil diecinueve

nadie hizo nada para corregir a este respecto este informe viene a decir gutxi gora behera que las inspecciones llevadas a cabo fueron conformes

no peligrosos en vertederos y que la autorización ambiental integrada de zaldibar es sólida y cumple con los requerimientos europeos

parece que no resulta ser suficiente cumplir con la normativa

también realiza unas observaciones respecto a que los vertederos son actividades donde el depósito de residuos impropios o la adopción de medidas de ingeniería inadecuadas

a la vista y las prácticas operativas pobres no van a poder ser detectadas

por muy frecuente que se realice la misma por lo tanto según la auditoría la responsabilidad debe ser del operador para cumplir con las condiciones de la autorización

y monitorizar sus operaciones e informar a la autoridad competente de los incidentes y problemas

la auditoría pretende establecer que quienes inspeccionan autorizan y administran no tienen responsabilidad política o administrativa y mucho menos penal pero vamos a ver es esta la finalidad de la auditoría limitar responsabilidades acotar a la empresa operadora cualquier responsabilidad

de la que estamos hablando fuera a dirimir responsabilidades políticas porque eso

en radio euskadi me deja usted perpleja lehendakari

la auditoría de la autorización ambiental integrada es la medida que usted toma para saber si existen responsabilidades políticas en esta catástrofe no sé a quién quiere engañar la auditoría viene a verificar el expediente de zaldibar y si lo que dicen los papeles es adecuado a la normativa y si la autorización ambiental integrada de zaldibar

ese informe creo que hubiera adivinado las conclusiones del mismo de ahí no iba a sacar usted ningún responsable político

y la de su gobierno eso lo tengo clarísimo pero bueno

ustedes y la mayoría que gobierna al que sustenta al gobierno bloquearán cualquier iniciativa

es otra cosa no queremos volver a sufrir un zaldibar dos o nada que se le parezca

estamos en la obligación de proteger el planeta proteger esta pequeña porción de territorio y a los ciudadanos que lo habitan y es un hecho que producimos muchos vertidos y que tenemos que gestionar de la manera más sostenible posible y zaldibar indica a las claras

y debemos mejorar mucho en esta materia debemos por tanto hablar debatir y acordar en esta materia de medio ambiente y lo que deberíamos hacer para gestionar los residuos no urbanos que producimos y sobre los que este gobierno tiene posibilidades y si hay que cambiar el modo de inspección para

pues habrá que hacerlo si no señorías la autocomplacencia nos va a llevar a revivir zaldibar en otro lugar en unos pocos años y si se han minusvalorado

debemos saberlo y si es preciso intervenir hagámoslo y por eso nosotros proponemos la creación de

izquierda unida y se la voy a leer para que ustedes la tengan en cuenta instamos al parlamento vasco poner a disposición de esta cámara toda la documentación

y un documento donde se recojan todas las actuaciones del gobierno después del accidente en un plazo de dos meses también

en materia de medio ambiente de una ponencia que realice un diagnóstico sobre la situación de los vertederos de residuos no urbanos en euskadi como el existente en zaldibar y elabore un informe sobre su funcionamiento y gestión

y que sirva de base para la elaboración de una ley de gestión de residuos y economía circular

señores ustedes crean ponencias

este caso los vertederos en euskadi es momento de crear una ponencia para que sepamos en qué estado están todos

vertederos por tanto me sobra tiempo pero creo que es suficiente para fomentar la creación de esta ponencia muchas gracias eskerrik asko larrea andrea

gertatu el derrumbe de un vertedero no es un suceso inevitable e imprevisible y no lo era desde luego tampoco en el caso del vertedero de zaldibar

y debemos exigir que se conozcan todos los hechos que se depuren responsabilidades y que las políticas de control del gobierno vasco sobre las actividades potencialmente contaminantes de

badaude el informe de la auditoría encargado

precisamente a eludir cualquier responsabilidad política a justificar lo injustificable entre otras conclusiones del informe se llegar a decir que controlar el vertedero prácticamente era una tarea imposible

era la verdadera responsable de cumplir con lo autorizado pero si esto si controlar la actividad de un vertedero es imposible entonces para qué sirve la función de control del gobierno contenida en la legislación

ni siquiera hace referencia a la directiva europea de residuos que prioriza la reducción la reutilización y el reciclaje y que señala como la peor de las opciones la incineración y el vertedero que son justamente las opciones preferidas de nuestro gobierno

por la dificultad de controlar los vertederos estamos convencidas de que el problema es creer que estas actividades industriales contaminantes pueden ser controladas con las

oculares periódicas cada seis meses o cada año

no nos veamos obligados a decir como mafalda paren este mundo que me quiero bajar

está claro que el desastre del vertedero de zaldibar gestionado por la empresa

al primer plano el problema de la gestión de los residuos industriales en euskadi de pronto la sociedad vasca algunos partidos políticos y las instituciones parecen haber descubierto que como país altamente industrializado

el vertido estas instalaciones son y van a seguir siendo necesarias si se quiere mantener la actividad productiva algo

ya conocíamos y ya estábamos trabajando sobre ello sin duda afrontar esta situación va a ser uno de los aspectos destacados

tremendamente complicada porque se van a mezclar los intereses de aprovechamiento político del desastre verter con la desconfianza

locales nada dispuestas a tener en su municipio los residuos que ellos mismos producen

ambiental responsable a un problema acuciante y todo ello en una situación económica delicada en la que habrá sin duda también empresas que no te serán responsables y que no estarán dispuestas a asumir

aprovechar la coyuntura económica propiamente dicha para no hacerlo el nuevo gobierno de coalición entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi es consciente de ello y ya se encuentra articulando desde el primer momento de la legislatura una estrategia de residuos que le permita afrontar

este problema de manera correcta y adecuada en sintonía sin duda con la política europea tratando de compatibilizar las exigencias ambientales con la

no es algo nuevo ya que el gobierno anterior trabajó profusamente en esta y en otras cuestiones relativas a lo que ahora nos ocupa

aprobadas en el consejo de gobierno durante la legislatura anterior de administración ambiental conservación del patrimonio natural y la ley de cambio climático

son sin duda claros ejemplos de ello es indudable que se requiere por ello diseñar un plan de residuos y de vertederos que tengan en cuenta todas esas facetas y prever los recursos que sean necesarios

y a medio plazo un plan que debe arrojar también el sustento de una base jurídica que derive en una ley

en la que la gestión de residuos quede perfectamente definida tal y como proponemos o proponíamos en la enmienda realizada a la pnl de podemos y que a buen seguro será tramitada legislatura un plan de gestión de residuos trabajado ya que tiene un horizonte a dos mil treinta que incorpora el análisis técnico de la situación de los residuos en euskadi tanto urbanos como industriales y que se basan en propuestas concretas y líneas de acción una estrategia que le permita también

y ante una oposición que va a seguir utilizando este

y que propicie la colaboración entre instituciones y empresas involucradas en el problema un plan que como decía ya está avanzado que ya tiene borradores un plan

de residuos en la ley que acabo de mencionar que habla o que sugiere la instauración de cánones de vertido

legal vía decretos para nuevos usos y prohibiciones de determinados

de inspección la instalación público privada de almacenamientos intermedios y de control de calidad de áridos tierras otras materias la instalación público privada de búsqueda de soluciones definitivas a los residuos plásticos la dotación de entidad jurídica

órgano de coordinación de residuos urbanos u órganos de coordinación de residuos la compra pública verde

y retorno etcétera etcétera en definitiva esta debe ser la base sobre la que se sustente la futura gestión de los residuos una base que una vez

proyecto de ley será debatida en la consiguiente ponencia y en la que todos los grupos parlamentarios podremos realizar las enmiendas oportunas ese es el marco en el que hay que trabajar por eso

aguardar a esa ponencia para que realicen las estimaciones y las enmiendas que estimen oportunas pero desde luego este gobierno y los grupos que

unas cuantas veces esa base ya está hecha ese trabajo ya está hecho todas las bases sobre las que se tiene que sustentar esa ley que nosotros hemos comentado está ahí sin duda alguna creo que en diversas cuestiones que se han tratado ya en la primera ronda de este debate

que cae por su propio peso ustedes nos han acusado de sustentar a un gobierno que no es transparente que oculta

que de las tantas solicitudes que se ha recibido que ha recibido este gobierno en la cual se solicita la información correspondiente

solicitudes los grupos parlamentarios han realizado diez peticiones que ya están contestadas firmadas por el señor barrio por el señor estarrona en fin por podemos por el señor hernández en fin todas ellas

con los plazos y con las solicitudes de información perfectamente definidas se les ha olvidado decir algunas cuestiones mencionan la auditoría lo han realizado los dos grupos que presentaban las iniciativas correspondientes

en fin la auditoría también dice que el gobierno actuó correctamente

que respondió en perfectas condiciones a todo lo que se le mandaba que aportó en todo momento toda la documentación necesaria tanto

judiciales que lo hizo exactamente igual que lo ha hecho con los grupos parlamentarios que han solicitado información señorías que la ley que la normativa no sea suficiente no quiere decir que este gobierno no haya cumplido con la ley y con su cometido

lo que no dice la auditoría es lo que ustedes quieren eso es lo que no dice la auditoría y parece que no les gusta ustedes se autoproclaman auditores ustedes ya están arrojando unas conclusiones que no son las que se ajusta a una realidad pero es que claro es que la realidad que existe

objetiva que está en esa auditoría que está en los juzgados que pedirán las responsabilidades correspondientes a la empresa responsable que ha generado ese

no es la realidad que ustedes desearían no es la realidad que ustedes han construido en su mente mala suerte

construir una normativa una ley que evite estas circunstancias y que ponga en manos del gobierno

para que ese control sea más estricto para que podamos concienciar a la ciudadanía a nuestras empresas que tenemos que dar un salto cualitativo en la gestión de nuestros residuos en eso está en este gobierno en cualquier caso

que si tienen algún tipo de duda y necesitan más información la soliciten esa es su labor

la de controlar al gobierno y la responsabilidad del gobierno será contestarles como ha venido haciendo hasta ahora y como sin duda no va a dejar de hacer nunca en cualquier caso este gobierno ya tiene contratado desde hace meses un equipo de catedráticos de alto prestigio para realizar un informe pericial

las causas que originaron el derrumbe espero que lo tengamos a la mayor brevedad posible para que ustedes

sigan aterrizando en una realidad que es la que es y no la que ustedes mentalmente

vale pero después hablaron los consejeros y las consejeras

y nadie reconoció ningún error por lo tanto eran unas disculpas que eran por nada

por lo tanto entiendo que a partir de ahí el gobierno piensa que no hay ninguna responsabilidad política y ahora la discusión esta que está habiendo sobre el informe de ricardo no la termino de entender

relacionada con las responsabilidades políticas que hubieran podido haber de la gestión previa de los vertederos en general de zaldibar en particular y

del directo digamos de la emergencia y las medidas que se tomaron después por lo tanto son cajones que son completamente separados iruditzen zait baita ere hemen beste arrisku bat dagoela

lo que se va a decidir dentro de x años en los tribunales

por esclarecer la responsabilidad penal sobre el propio derrumbe zaldibar pero entiendo que esto no quita para nada el análisis y el esclarecimiento de las posibilidades responsabilidades políticas que pudiera haber

de toda la política inspección y control que hubo antes

esan zuen que no había habido tacha que no había habido ningún tipo de tacha eta hori mantra bat bezala gero

consecuencia del incendio entonces hay un montón de cosas aquí que evidentemente a nuestro entender tienen tacha

muchísimas más ahora no me voy a poder detener y ya

cuando llegue el momento de la petición de la comisión especial de investigación

toda la cuestión de la famosa inspección de junio y julio de dos mil diecinueve pero también está toda una política anterior que venía de muy atrás y que estaba basada básicamente para facilitar vamos a decir que fuera muy lucrativo

sirviera como una especie de empuje de competitividad o de reducción de gastos para algunas

la jerarquía de residuos que nos viene dada de la unión europea etcétera ezta

zer argitu ezta todo lo relacionado con los sobrepasamientos de los límites de la autorización ambiental integrada los porcentajes y los tipos de valorización con la problemática de las cantidades gigantescas de lodos

que se estaban utilizando y que se estaban mezclando en contra de las directivas europeas ahí tenemos muchísimo que aclarar y ahora mismo no tengo tiempo utzidazue

usted hablaba de la de la información que ha dado puntualmente el gobierno no es así no es así o sea ya desde el día diez febrero cuatro días después pedimos los expedientes completos

y la respuesta del departamento de arriola fue que como el volumen de información era muy grande

ocho meses después a decir que necesitan tres meses para darnos toda la información no solo eso sino que se les han pedido los informes completos de la inspección los informes completos de los residuos que iban a verter y nos han mandado nada más con unas memorias sucintas

entiendo que faltando al deber de entregar toda la información y si usted lo que me viene a decir o en lo que viene a basarse para defender el trabajo del departamento es

son las leyes medioambientales cuáles leyes medioambientales las cero leyes medioambientales que se aprobaron en la legislatura pasada ese es el ejemplo yo creo que va usted mal encaminado azkenekoz

geratu zaigun fenomenoa izan delako el fenómeno por llamarlo de alguna manera de la paradójica unidad de estrategia bi ekimen

besteak beste eredu jasangarriago batetarako bidea egiteko expresiones de voluntad de acuerdo a mansalva y luego

eta erdibideko bat egitea oso erraza zela en nuestra enmienda nos acercábamos tanto a lo que podemos solicitaba que hasta yo que por llevar unos cuantos años dedicada a esto de la política vasca o así

que soy bastante descreída de casi todo hasta yo creía que llegar a un acuerdo iba a resultar difícilmente soslayable pues resulta que no

por no poder despegarse del acuerdo lo cual da la medida de lo que valen las declamaciones de buena voluntad políticamente correctas

el pleno de política general y utilicé unas palabras que dejó escritas javier landaburu que fue burukide del euskadi buru batzar en referencia a lo que él conoció en el congreso de los diputados allá por el lejano mil novecientos treinta y tres en plena república española

esos parlamentarios en los tiempos en los que yo lo era votan generalmente no en razón de la bondad de los proyectos que se les someten

que es lo que está pasando si se trata de tumbar a un gobierno

no pasarán eso indudablemente no es legislar es hacer política pero de la mala y no tengo excesivas dudas de que si landaburu viera lo que hemos visto

lo resumiría en cuatro palabras política de la mala eztabaidarako alderdi popularraren ekimena bakarrik geratu da

tengo muchas cosas que decir lo primero por lo que voy a empezar es por decir que no se sientan

y menos por mí porque soy tan vasca como ustedes aunque no milite en el partido nacionalista vasco lo siguiente

que quiero puntualizar es que vengan ustedes a la buena política y qué miedo hay

que se opongan a la ponencia ni gestión diligente ni responsabilidad

ninguna comisión de investigación y ahora tampoco una ponencia que trabaje para evitar la repetición de la catástrofe nosotros hoy no hemos traído aquí

momento ni hemos dicho

esto lo han dicho ustedes nosotros queremos que aparezca el cuerpo de joaquín beltrán cuanto antes

lo que también quiero decir es que tanto desinterés

acabarán convenciéndonos de que tienen más intereses propios o de amigos muy amigos en zaldibar de los que pueden confesar y le diré al señor

varias veces se les ha caído un vertedero entonces

se podía haber evitado en ese ir y venir la delantera que nos llevaban lo podían haber evitado pero no

proposición no de ley para hablar de lo que sucedió en zaldibar sino para que no vuelva a suceder bienvenidos otra vez les digo

que sería votar a favor de la transacción acordada

abar la cuestión es la utilización precisamente de las auditorías para eludir cualquier tipo de responsabilidad porque lo importante de estas auditorías

y hay una pregunta que es clave sencilla muy sencilla y que no tiene respuesta todavía a día de hoy y es la siguiente por qué no se tomaron medidas cautelares y se cerró el vertedero en su día por ejemplo

que ellos para cuando nosotros vamos ellos van y vuelven desde luego vuelven y vuelven a fallar una y otra vez en la capacidad de control de inspección y de sanción de los vertederos que funcionan mal

se diría que la intervención de los partidos que sustentan al gobierno vasco

a decirse sobre zaldibar se resume en una cosa y es que cualquier iniciativa

la gestión del gobierno vasco en esta materia está vedada y que utilizarán además su rodillo para que nunca jamás

b de bochorno al escuchar estas cosas eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea euskal sozialistak

lamento mucho que no asimile los resultados electorales pero en democracia

determinado resultado y cuando hay dos partidos que aunque provenientes de tradiciones diferentes se ponen de acuerdo conforman un gobierno

la democracia lamento que no le guste y lamento que piense

no se pueda debatir porque nada más lejos de la realidad mire aquí hay un hecho tangible hoy usted aquí ha estado debatiendo sobre una cuestión concreta por tanto

la democracia afortunadamente funciona tal y como debe y efectivamente las auditorías están para arrojar conclusiones las auditorias

lo que ha hecho otra cosa es que a ustedes no les gusten los resultados de esa auditoria porque no coinciden con lo que ustedes desearían pero eso no es un problema ni de este gobierno ni de nuestro partido

suyo hablaba la señora larrea de la buena política en fin podría preguntarle si la buena política es la de la señora ayuso pero creo que es un debate que no viene

y evidentemente la ponencia que ustedes proponen no es para hablar de lo que pasó sino para intentar poner palos en las ruedas y efectivamente torpedear a este gobierno nosotros efectivamente claro que queremos una ponencia

la base de lo que tiene que ser una futura normativa claro que nosotros para cuando ustedes van nosotros hemos vuelto el único partido que ha puesto encima de la mesa las bases el plan sobre el que se debe de sustentar la futura ley hemos sido nosotros y sabe por qué porque luego hemos en cualquier caso hoy aquí los tres partidos de la oposición que han intervenido han calificado de nefasta de horrorosa la gestión de falta de control oigan cómo es posible que ningún partido haya cuestionado hasta el momento hasta el derrumbe del vertedero de zaldibar ni la gestión

cómo es posible cómo es posible que no lo hayan denunciado cómo es posible que no hayan traído aquí iniciativas parlamentarias para impulsar políticamente la mejora de esas herramientas cómo no lo han denunciado hasta la fecha a hechos vistos podemos sacar conclusiones el primer interesado en mejorar esas herramientas es el propio gobierno traigan propuestas por qué no lo hicieron antes por qué vienen hoy a denunciar una situación que ustedes tampoco detectaron por qué no lo hicieron díganmelo señor otero

unas cuantas que los protocolos son mejorables indudablemente pero como le decía a hechos vistos todos podemos sacar conclusiones el primero que las ha podido sacar es el propio gobierno

que se pueden mejorar los protocolos claro que en aquel momento quizá se podía haber tenido otro protocolo que hubiera mejorado esas condiciones pero se actuó con urgencia

fue el exconsejero señor arriola hoy aquí presente

la normativa las mejoras de control las autorizaciones ambientales indudablemente y en eso va a estar el gobierno en fin claro el gobierno aprobó tres leyes en su consejo el gobierno hizo lo que tenía que hacer y cumplió con el trabajo

señor otero cuál es su modelo de gestión de residuos quizá sería interesante que viniera aquí

el de la imposición de un sistema que rechazó la sociedad guipuzcoana cuál es el de la importación de residuos a otras comunidades autónomas con el coste económico que generó y que obligó

a seguir desembolsando un dinero ingente por el caos que ustedes mismos habrían producido cuál es su sistema de gestión de residuos el de la apertura

están denunciando y que sin embargo proponían en las juntas generales

por haber rescindido un contrato para la construcción

de gipuzkoa y que fue democráticamente aprobado por la cámara guipuzcoana quizá sería interesante que viniera usted aquí

bueno erantzuna berriro veo que hay ganas de juego sucio y de

había y sigue habiendo en zaldibar como para que empecemos con estas si tenemos ocasión de hablar de modelo de residuos

lo que ha hecho es mejorar de una manera muy ostensible con los parámetros de las directivas europeas la gestión de residuos que contrasta bastante con lo que podíamos llamar el modelo zaldibar por decirlo así en pocas palabras

arriola fue el primero que fue allá yo esto se lo pongo en duda repase la hemeroteca arriola no apareció en zaldibar

no apareció hasta el día diez y además hizo una jugada que fue a mi modo de ver bastante poco elegante que es registró una petición de comparecencia petición personal porque él era el primer interesado en que se aclarara esto

el lehendakari urkullu iba a convocar elecciones con lo cual su petición de comparecencia

decaía digamos entonces no creo que tenga usted mucho que sacar pecho sobre lo que hizo el señor arriola esos primeros días que en cualquier caso me gustaría hablar

que la firma un tal ricardo cía que supuestamente

creo que es así y quien crea que no que lo diga son auditorías

técnicos y personas no solo habituadas a hacer estas clases de trabajos sino con gran conocimiento técnico conocimiento técnico

portavoz del partido popular le tengo que reconocer que yo parlamentaria sí que soy pero no tengo y que a lo mejor siendo injusta extiendo

pero ha dicho si no hubiera tenido en mis manos esa auditoría

y sería algo así no sé y yo sería capaz de adivinar y hasta de redactar

de acierto cuáles serían las conclusiones que el partido popular redactaría en una eventual comisión de investigación

dice eh bildu etcétera la cuestión es que

antes he comentado se me ha olvidado quitarme la máscara barkatu lo de la paradójica coincidencia del bloque

durante muchos meses y me temo que seguiremos viendo
cómo va a funcionar eskerrik asko arrizabalaga andrea

señalábamos también la necesidad de corregir la falta de visión socioeconómica necesaria de las ayudas al no verse modificado la forma de pago de las mismas

lo que supone que las familias tienen que mantenerse sin ingresos

en resolver la tramitación correspondiente algo imposible algo imposible para las familias más vulnerables para las familias sin ahorros que quiero recordar que en araba gipuzkoa y bizkaia eran cada vez más

ya antes de la pandemia qué decir de aquellas mujeres de aquellas familias monoparentales encabezadas por una mujer en situación precaria la verdad es que este punto nos llamaba poderosamente la atención sobre todo teniendo cuenta que las ayudas esas ayudas excepcionales

más vulnerables en fin euskal herria bildu presentó entonces una iniciativa para corregir esas disfunciones que fue rechazada por los grupos que sostienen al gobierno

salbuespen neurrien berri eman zigun orduan nos decía entonces que nos enfrentamos a un panorama incierto con muchas incógnitas que era difícil de responder

y nos decía que sabía que probablemente las medidas adoptadas hasta el momento no serían suficientes y por ello pedía al gobierno vasco que tal y como recoge el programa bizi berri bizi berri y leo textualmente el primer objetivo de las políticas sociales sea ayudar mediante medidas de conciliación y cuidado formal

la incorporación progresiva de todas las personas trabajadoras a sus puestos de trabajo y que estudie la adaptación en cada fase de la pandemia de las ayudas a la conciliación

garantizando siempre la corresponsabilidad en el cuidado de menores y las personas dependientes decía que

y atentas para ir adecuando esas medidas pues todo eso nos lo decían pero varios meses después cinco meses después pues nada de nada

de esa adaptación de las medidas de conciliación a las diferentes de las fases de la pandemia nada de nada las familias han tenido que afrontar a pulso la segunda ola de la pandemia sin ese acompañamiento al que se hace referencia en el programa bizi berri nada de nada bizi berri bai baina zaharrak berri asmoak bai baino ekintza

edo egokitzapen ariketarik ere ez y por cierto tampoco he encontrado ninguna mención a la revisión de estas ayudas en el acuerdo de gobierno

es que en mayo pedían al gobierno que estudiara la adaptación de las medidas

no sabemos si es porque porque nadie ha compartido con nosotras esa información si ese estudio está ya realizado si está concluido

no sabemos cuándo plantea hacer esas adaptaciones la realidad lo que sí sabemos es que

y las necesidades las tenemos encima ya y que el programa bizi berri se presentó en mayo

y que han pasado cinco meses no hay ninguna manifestación del gobierno en este sentido y su enmienda tampoco nos aclara nada gure proposamena oso argia eta

eta zentzu honetan nik uste dut bi gauza oso argi esan behar direla el no querer reconocer el carácter retroactivo de las ayudas equivale a decir que el gobierno vasco escurre el bulto y que deja sobre las espaldas de las familias todas las consecuencias de la segunda ola del covid ni más ni menos y en el

pese a que este es un problema más que conocido lo que equivale a decir es

no es cosa de pobres y que para conciliar hay que tener pasta y en este punto nosotras nos hemos puesto inflexibles y nos parece que es un tema que ya no podemos pasar más porque este como ya

yo me voy a saltar la descripción gráfica de la más que complicada situación en la que se encuentran muchas familias a la hora de conciliar y sobre todo en esta situación porque bueno creo que la señora kortajarena ya ha hecho

que somos conscientes de ello y creo que seguramente a todas y a todos nos toca nosotros pensamos

que las medidas excepcionales para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar

lo que se ha venido llamando el plan me cuida nosotros pensamos que han supuesto una primera y rápida respuesta para paliar las dificultades adicionales

complicada situación de la conciliación en nuestra sociedad pensamos que la posibilidad de acogerse a esas reducciones de jornada excepcionales aprobadas y que han sido prorrogadas hasta el final de año o hasta el treinta y uno enero si no recuerdo mal

y una buena noticia y pensamos que hay que defenderlas y mantenerlas todo el tiempo que sea necesario y por eso lo nombro en este debate

que se nos trae hoy pero también vamos a añadir otra cosa desde nuestro grupo

somos conscientes de que son insuficientes y que se debe ir más allá

que el gobierno del que formamos parte en el estado está haciendo un buen trabajo en este sentido y la ministra que pertenece a mi organización política está haciendo un excelente trabajo pero pensamos que se debe ir también más allá en el tema de los cuidados

de la pandemia por ejemplo para que esto no suponga una merma en los ingresos salariales de las y los trabajadores porque hay muchas familias para los que esos ingresos

lo tienen realmente muy complicado para acogerse a determinadas medidas que de por sí son buenas así que a nosotros no se nos caen los anillos en reconocer que a pesar de los buenos pasos dados y en la buena dirección por parte del gobierno

tenemos que ir más allá pensamos que debemos transformar en derechos permanentes muchas de las medidas que en estos momentos se han sacado adelante de forma excepcional

a la mejora de derechos laborales relacionados con la conciliación tenemos herramientas públicas y tenemos competencias en este parlamento o mejor dicho en el gobierno vasco

competencias públicas que debemos utilizar para mejorar y garantizar la conciliación de las y los trabajadores medidas que hacen más efectivas las excedencias

dependientes tanto las ordinarias como las por razones de covid y entre ellas

de veintidós de abril a la que hacía referencia la señora kortajarena y a la que

del grupo eh bildu nosotros estamos de acuerdo con el grupo proponente

y las tareas de cuidados de las familias trabajadoras ya trajeron

a la diputación permanente hace unos meses y desde luego contaron con nuestro respaldo y con nuestro voto afirmativo

de los grupos que apoyan al gobierno que apoyaban al gobierno y que apoyan al nuevo gobierno que es el mismo

y señalamos que estas ayudas tienen que estar disponibles para todas aquellas personas que se puedan acoger a las medidas laborales que se han habilitado desde el ministerio de trabajo

a reducciones de jornada y a todas supone hacerlo en nuestra opinión desde el principio

para no generar discriminaciones y es decir de ahí la importancia del carácter retroactivo

medidas excepcionales en el ámbito laboral nosotros respaldamos las medidas concretas que planteaba en su iniciativa original el grupo

de la iniciativa del grupo original y para eso pues podíamos haber hecho como la diputación permanente y simplemente votar a favor y punto pensamos que es muy importante y ha sido lo defendí también yo en la diputación permanente la cuestión del pago único anticipado

porque para muchas familias es fundamental porque muchas familias si no reciben el dinero si saben que no van a recibir el dinero de una forma prematura no se van a acoger a reducciones de jornada que les supongan una merma en sus ingresos salariales en los ingresos que necesitan

lo permiten las medidas pero hay que seguir comiendo y por lo tanto eso es nos parece muy importante garantizar la dotación presupuestaria necesaria para que nadie se quede sin esas medidas nos parece

discriminaciones y que además avanza pues en clave de derecho para este tipo de ayudas igual lo mismo pasa

las ayudas algo que es especialmente necesario para las personas más vulnerables para aquellas familias que menos ahorros tienen para los que salarios más precarios tienen etcétera y la medida de ampliar a los dieciséis años seguramente es la menos importante pero cuando hablamos de medidas excepcionales y por razón de enfermedad

que a los dieciséis años tener que cuidar a una persona que tiene quince

nos parece que está ajustado que está bien y por supuesto incorporar la línea de contratación de personal de cuidados nosotros pensamos que en estos momentos esto es urgente estamos de acuerdo con esta medida sobre todo en la actual situación donde las familias no pueden esperar

aquí hay una cuestión de fondo que no se resuelve solo con ayudas a la contratación de personal de cuidados nosotros pensamos que esto es positivo nosotros

de fondo se tiene que abordar con otro tipo de medidas y medidas más potentes porque pensamos que los cuidados y los cuidados de las personas dependientes de menores etcétera debería ser una obligación social y no un problema del ámbito

subvencionado una obligación del conjunto de la sociedad y por lo tanto defendemos establecer también herramientas necesarias para que los cuidados sean garantizados

pública también creemos que es necesario un sistema público de cuidados

ha venido a ponernos sobre la mesa de relieve algo que ya estaba

y pensamos que desde lo público se debe garantizar ese derecho es una tarea que nos tomamos muy en serio en elkarrekin podemos izquierda unida y en la que somos conscientes que hay que escuchar también a todas las partes implicadas y por eso precisamente no queremos correr y hemos presentado también una iniciativa que se va a discutir

una ponencia para abordar el sistema de cuidados

adoptar muchas medidas desde el ámbito laboral para mejorar y garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar y yo desde luego

que desde el ámbito laboral se aborden estas cuestiones pero la tarea de cuidados de personas dependientes pensamos que no se resuelve solo con reformas

que los cuidados son un derecho y tenemos que conquistar ese derecho luego discutiremos sobre cómo tiene que ser el modelo

pero en la iniciativa que discutimos hoy estamos hablando de unas ayudas muy concretas nosotros nos sumamos a la iniciativa del grupo proponente hemos llegado con ellas y con ellos a un acuerdo que si fuera asumido al menos parcialmente

estamos seguros que sería una mejora muy importante para las familias trabajadoras de este país en esta situación y además estamos convencidos de que no estamos hablando de montos económicos inasumibles todo el mundo está muy contento de que podamos ampliar los márgenes en su día con el déficit etcétera ese aumento de márgenes tiene que servir precisamente para este tipo de medidas y no para otras

aurkeztu genituen decía que para el partido popular la pasada legislatura

esta legislatura la coalición partido popular ciudadanos hemos considerado

alguna iniciativa en relación con esta cuestión como puede ser la elaboración por parte del gobierno de un plan que aborde el reto demográfico

por que continúe usted en el gobierno pero creo que también pues puede ser bueno que continúe la misma persona porque sabe lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho y creo que ha habido carencias

por parte del propio lehendakari con promesas incumplidas cuántas veces le hemos oído hablar del famoso la famosa estrategia

en esta cámara se demoraron los marcos de aprobación que recogen las medidas concretas de apoyo a las familias la evaluación del tercer plan llegó tarde

hubo un retraso en la aprobación de los instrumentos que son necesarios para implantar herramientas específicas

que regula las excedencias por paternidad por simplificarlo llegó también tarde un año y medio después que usted lo anuncio además en el pleno de reto demográfico también pues no sé tengo que decirlo aquí y es una cosa que el partido popular lamenta

adquiridos en relación a este grupo en las partidas presupuestarias concretas de apoyo a las familias precisamente también porque esas herramientas esos decretos pues no se aprobaron o no se impulsaron con la celeridad debida

regulan medidas dirigidas a las familias para responder a la situación del covid son medidas como todos sabemos de acuerdo a lo que se especifica en la orden de carácter temporal y excepcional actualmente no están en vigor porque

desde la coalición partido popular grupo popular el grupo parlamentario popular ciudadanos consideramos

la situación de vulnerabilidad la situación de necesidad y en ese sentido yo creo que desde el departamento que dirige la señora artolazabal pues yo creo que hay una necesidad de dar respuesta a las peticiones y sobre todo a una demanda que sigue habiendo ahí en relación a paliar esas situaciones de vulnerabilidad que pueden estar acompañando a muchas familias vascas de ahí bueno la oportunidad de esta iniciativa nosotros la hemos enmendado

se ha llegado a una transacción por parte del grupo elkarrekin podemos y bildu que nosotros vamos a apoyar porque en principio recoge

que obviamente se revisara

entendemos que había algunos aspectos que son susceptibles de mejora todo lo que tiene que ver con la retroactividad de estas ayudas la forma de pago el importe de las mismas y una cuestión que nos parece importante y que también lo han hecho llegar los colectivos afectados que quiero también pues agradecer a las distintas asociaciones y personas que trabajan en el tercer sector las aportaciones la posibilidad de incorporar una línea de contratación de personal de cuidados entre otras por lo tanto estos aspectos que planteábamos en nuestra enmienda a la totalidad se han recogido y en ese sentido vamos a apoyar la enmienda de transacción tengo que decir que aunque bueno pues también hemos hecho intentos y todos y yo creo que bueno pues hay queda el esfuerzo realizado por todos

acercar posiciones con el gobierno pues no ha sido posible

una cierta posición de autocomplacencia en esta materia y yo no digo que se autoenmiende en relación a

del mismo color y los gobiernos eso no lo suelen hacer

que se dediquen ustedes a aplicar el rodillo y simplemente aprobar sus enmiendas y sobre todo en políticas que son pilares

en ese sentido creo que su enmienda se queda corta no hace referencia a la orden

tenemos la convicción de que hay que descender un poco más en las políticas de familia es decir llevamos ya mucho recorrido hay instrumentos encima de la mesa es verdad que algunas han llegado tarde

algunos han llegado tarde pero no nos pueden presentar simplemente una enmienda en la que se diga que se adapten las ayudas a la conciliación al objeto de dar respuesta a las necesidades que pueden surgir en las familias vascas yo creo que esto necesita respeto a las personas que lo están pasando mal una mayor

de menores y mayores dependientes para que este cuidado pueda ser compatible con la vida laboral de los miembros de la familia yo creo que también esto es pues un pronunciamiento pues excesivamente genérico

en la situación que estamos y sobre todo cuando digo este grupo en particular ha presentado muchas iniciativas la pasada legislatura reivindicando aspectos concretos creo que hoy tenemos una iniciativa que

presidenta desde luego indudablemente hemos debatido en numerosas ocasiones en este parlamento sobre

políticas de apoyo a la familia en la anterior legislatura en la onceava legislatura y también

obviamente se han producido una serie de efectos como consecuencia de la pandemia que

poner en valor también de dónde partimos en la legislatura pasada y en la legislatura pasada se adoptaron por parte del gobierno numerosas medidas con el fin de favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar

se recoge la necesidad de atender los cuidados el gobierno vasco aprobó la estrategia del plan operativo para reducir la brecha salarial en euskadi dentro del consejo de gobierno de noviembre de dos mil dieciocho y se aprobó el cuarto plan de apoyo a las familias y a la infancia

también tuvimos un monográfico específico sobre familia en marzo de dos mil dieciocho y todo lo acordado dentro monográfico se recogió dentro del cuarto plan de apoyo a las familias

sobre medidas para adoptar en apoyo a las familias en nuestra comunidad autónoma de una forma más amplia dentro de dicho pleno

eso es importante porque los réditos de las estrategias se consiguen con el paso de los años y eso exige una estrategia global que no cambie

para que los resultados sean lo más largos posibles y también implica la necesidad y va unida a un cambio de cultura cultural y social dentro de las empresas en el ámbito de la corresponsabilidad

parlamentario los socialistas vascos hemos reiterado en numerosas ocasiones que no podemos basar esa estrategia global sobre políticas cortoplacistas basadas fundamentalmente en el asistencialismo

ayudas a la conciliación sino que por el contrario han de abarcar aspectos más amplios y debemos avanzar hacia un modelo europeo partimos también que somos la comunidad autónoma con más ayudas sociales destinadas

ayudas que se van incrementando cada año y contar con una estrategia global no impide

más allá en la ayuda a la conciliación porque dentro del mismo plan

en esta línea al modelo europeo es importante poner en valor de dónde partimos pero también

y los efectos que ha tenido sobre las familias vascas y es por lo que se aprobó las ayudas establecidas en la orden de ocho

consejería de empleo y políticas sociales que regulaban las medidas específicas de apoyo a las familias para poder responder al impacto

estas solicitudes se pudieron presentar una vez finalizado el estado de alarma

para responder a las necesidades de conciliación de las familias y adaptar la normativa a esas necesidades en nuestra enmienda a la totalidad la enmienda presentada por el grupo nacionalistas vascos y el grupo socialistas se insta

medidas de adaptación de estas ayudas a la conciliación con el objeto de dar

sufrir las familias vascas derivadas de todo el impacto del covid diecinueve y también garantizar el cuidado corresponsable de menores mayores dependientes para que este cuidado pueda ser compatible con la vida laboral de los miembros de la familia hemos hecho un esfuerzo en intentar llegar a transacciones

proponente como con los otros grupos de la cámara se ha hecho un esfuerzo y no hemos intentado directamente el decir bueno nosotros tenemos esta enmienda saben los grupos proponentes que sí hemos intentado

a veces se consigue y a veces no porque se tiene la intención de llegar a un acuerdo pero en ese acuerdo pues si no se está de acuerdo en todo lo que los grupos proponentes

no se pueda cerrar y culminar ese acuerdo pero eso no quita

necesarios para conseguir llevarlo a cabo dentro de la iniciativa presentada por el grupo proponente se recogen como

o incrementar la dotación económica de las mismas el gobierno vasco

tiene que valorar qué adaptaciones son las más convenientes en este momento y este cambio desde luego implica mucha complejidad por ejemplo el caso de poder

implica una complejidad y unos problemas de gestión que evidentemente

que evaluar y por lo que respecta al incremento de cantidades nosotros hemos puesto de manifiesto que la realidad es que

no ha habido un problema de falta de dinero sino todo lo contrario pero bueno se tiene que estudiar y

se podría replantear si no en si se quisieran sacar de nuevo las mismas

por lo que ante la situación cambiante incierta en la que nos movemos nosotros en nuestro primer punto hablamos de adaptar esas necesidades existentes

el grupo proponente a que esas ayudas se extiendan hasta los dieciséis años bueno pues habrá que ver o habrá que estudiar si eso se considera

ver a ver hasta qué edad puede ser la mejor por qué dieciséis por qué no catorce por qué no otra edad que se pudiera definir como más conveniente es por ello por lo que al final no hemos podido llegar a pesar de los esfuerzos

nosotros vamos a apoyar nuestra enmienda a la totalidad en el intermedio hemos ido intentando ampliar la misma no ha sido

apoyaremos la enmienda a la totalidad inicialmente presentada

eta erantzun egoki bat emate aldera en coherencia con ello las medidas específicas que en el ámbito de apoyo a las familias se han considerado más adecuadas

dirigido a las personas trabajadoras en situación de trabajo activo que acrediten que como consecuencia directa de las actuaciones y medidas adoptadas

hayan tenido que asumir los deberes de asistencia atención y cuidado de sus hijos e hijas por razón de su edad

que hayan resultado afectadas por el coronavirus debiendo prestarse especial atención en este último caso al colectivo de las personas mayores conformado por los abuelos y las abuelas por ser uno de los colectivos más vulnerables frente al coronavirus y esto es por lo que se materializó el decreto la orden perdón

utzi behar izan zuten langileen soldata murrizketak zekarren diru sarreren galera y de otro lado y en relación a las personas trabajadoras en situación de excedencia laboral

disfrutados por las personas progenitoras flexibilizar la exigencia de que la persona progenitora que no esté en excedencia deba estar en situación activa de empleo durante todo el periodo subvencionable en aquellos casos en los que habiéndose incorporado a su actividad laboral y estando en situación de alta

haya visto suspendido su contrato con motivo de las distintas actuaciones y medidas puestas en marcha para combatir y gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus

que las ayudas no se solicitan y usted no ha pensado que quizás

o como se mencionó aquí en las numerosas ocasiones que hemos tenido para discutir este tema esta puede ser una de las razones que hace que las personas más vulnerables no puedan no puedan no tengan igualdad de oportunidades para acceder a estas ayudas es que son

algo que es conocido objetivado contrastado y compartido y digo compartido porque la señora sánchez ha mencionado el monográfico de familias y este grupo acordó con todos los grupos de la cámara incluidos

y con el gobierno una revisión de estas ayudas precisamente en relación a este tipo de aspectos a la forma de pago a la titularidad

ustedes se comprometieron a hacerlo y llegó el plan de familias y ese plan de familias no recogía esa revisión y lo volvimos a traer a debate y ustedes dijeron como hoy ha dicho la señora sánchez que las estrategias no se pueden modificar

en contra pero la realidad es que ese problema de diseño que impide que miles y miles de personas en situación más vulnerable puedan acceder a este tipo de ayudas y que hace que estas ayudas tengan un sesgo socioeconómico bastante importante

siguen vigentes ustedes las conocen y las siguen manteniendo porque no las han modificado eta zein da zuen eskaintza zehazki

etorriko dena noiz noiz eta begira el tema de la retroactividad este es el periodo de la pandemia que ha estado cubierto con las ayudas

de esto estamos hablando cuando hablamos de retroactividad y desde luego de la forma de pago creo que ya es algo de lo que ustedes no se pueden escaquear nire ustez

esaten zuen andereñoak el que no haya entendido que levante la mano y levanta la mano manolito

no has entendido y responde manolito desde marzo hasta ahora nada

primero para aclarar alguna cosa a la señora garrido que yo no he venido

porque esta iniciativa está directamente relacionada con esas medidas excepcionales con esas reducciones de jornada no sé si se ha leído usted supongo que sí espero que sí el decreto

y ahí encontrará usted no sé cómo está redactado no sé cómo se dice

pero cuestiones subvencionables precisamente está hablando de esas reducciones y por eso a mí eso me parece importante y fundamental y decirle también a la señora sánchez porque yo creo que ha dicho usted una cosa

es muy importante dice se han presentado menos solicitudes no sé cómo lo ha dicho si

de que estas ayudas están mal diseñadas porque nosotros no nos creemos

de las familias en estos momentos sobre todo en estos momentos con esta pandemia este tipo de ayudas para la conciliación si ya en situación normal es muy complicado para muchas y muchos trabajadores acogerse a una reducción de jornada para los cuidados aunque sea un derecho aunque sea un derecho que tú te plantas en la empresa y dices yo me acojo a esta reducción de jornada sabemos que eso no es tan sencillo

sabemos que a veces hay trabajadoras y trabajadores

muy difícil que dejen de hacer el trabajo que están haciendo porque no se va a poder sacar adelante por lo tanto no es tan fácil y por lo tanto nosotros pensamos que

a este tipo de ayudas y sobre todo en las familias con menos recursos pues es el de las cantidades económicas y el que cubra a todo el mundo y otro del que hemos hablado antes que es el del pronto pago o como quieran ustedes llamarlo porque

mi salario que lo necesito para salir cada mes y me dicen que la ayuda que me van a dar me la van a dar

acoger a esa reducción y eso lo sabe la gente pues la gente no se acoge a esas reducciones y la gente no pide las ayudas

a ese tipo de medidas y por eso pues a veces no hay tantas solicitudes

que incluir medidas concretas es bueno y es necesario nosotros podemos entender que ustedes que el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi que apoyan al gobierno entendemos que no puedan firmar determinadas cosas

pero pensamos que en una cuestión además como esta que se viene debatiendo también

si realmente la voluntad expresada también por el señor urrutia es de mejorar en esa dirección y la dirección en la que dicen en su enmienda este tipo de ayudas pensamos que ya era momento

algunas de las cuestiones concretas algunas yo he estado en la negociación hemos estado antes ahí dentro yo creo que sí ha habido voluntad de negociación miren el único que no ha tenido voluntad de negociación soy yo lo reconozco porque yo he dicho nosotros estamos de acuerdo

si llegan ustedes a un acuerdo nosotros lo firmamos y yo creo que ha habido voluntad de acuerdo pero había cuestiones que sus grupos pues no están dispuestos a oponerse al gobierno y entiendo que esto es porque el gobierno pues prefiere tener las manos libres para ir haciendo lo que les vaya pareciendo que no tener una pnl que tampoco es una cosa del otro mundo pero que no tener una pnl aprobada por

que le diga que por favor tiene que hacer ya estas cosas yo creo que eso es lo que ha pasado y seguramente detrás de esto pues al final está el de

y con las noticias que estamos teniendo hay recursos para este tipo de cosas y además sobre todo cuando se nos sigue negando a muchos el debate

zure baimenarekin eserlekutik egingo dut bueno señora consejera yo esta vez le vuelvo a pedir valentía ambición y sobre todo liderazgo liderazgo para asumir

en ese sentido usted lo sabe nosotros no hemos estado de acuerdo con las políticas de familia que ustedes han o pusieron en marcha o mejor dicho porque no pusieron en marcha muchos de los compromisos que ustedes mismos

creo que es momento para ver el escenario que tenemos que creo que también ustedes son muy conscientes y en ese sentido y viendo obviamente con el rodillo ahora de la mayoría del

esta enmienda de transacción no va a salir pero creo que merece la atención aunque no se vaya a aprobar creo que la enmienda de todos los grupos de la oposición esta vez unidos

una vez más la pasada legislatura hubiera sido determinante ese acuerdo que ustedes le hagan un poco de caso

muchas familias que lo pueden estar pasando mal es revisar

esa orden estaba vinculada a la vigencia del estado de alarma el estado de alarma ha finalizado pero no ha finalizado la situación de muchas familias que lo están pasando mal que están en una situación de vulnerabilidad y que están en una situación excepcional por lo tanto
que mire también este acuerdo con un poquito de atención besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko

sí desde el escaño bueno yo he indicado en mi primera intervención que evidentemente nosotros enmienda a la totalidad hacíamos referencia a la importancia que le dábamos

de adaptación pero para esa adaptación se tiene que evaluar se tiene que explorar

de sacar esas ayudas de la mejor forma posible y donde se tiene que flexibilizar yo no he dicho en ningún

yo lo que he dicho que para conseguir unos objetivos a largo plazo

las estrategias en estas materias sino que tienen que ser políticas que en el grueso fundamental se tienen que mantener

para que los efectos que quieres conseguir con esas estrategias se puedan conseguir

que no sean modificables en algún momento es que no he dicho eso son dos cosas completamente distintas y los expertos en estas materias

con ese planteamiento y nosotros hemos sido claros hemos hecho el intento de llegar a ese acuerdo no lo hemos

desde luego eso no quita para que no se siga estudiando y viendo cuál puede ser la mejor solución

a la situación que se plantea a las familias en este momento y por tanto

gaurko egunean señor hernández hablaba usted de que

si acaso fuera asumido parcialmente pues que sería un gran avance pues me parece una manera correcta de verlo porque creo que parcialmente

sí que estamos de acuerdo en muchas cosas y tal y como he dicho anteriormente tal vez debemos cambiar algunas

de trabajo de relación para poder llegar a acuerdos en un futuro a mí me parece bien que cada uno tenga que defender a los suyos

con todos los respetos y no seré yo quien cargue contra otra administración porque creo que no estamos en un momento como para ello pero hombre el plan me cuida

luego no se compensan y tal y ahí tiene sus problemas tiene sus problemas de dotación económica

que cada uno tenga que defender a los suyos y me parece que es muy estimable por su parte señora garrido una cuestión de orden y de forma porque la legislatura pasada tuvimos

usted cuando debate en este tipo de debates debate conmigo y no con la señora consejera ya sé que un servidor no llega al nivel de su señoría pero debate conmigo no con la señora consejera si quiere debatir con la señora consejera le interpela pero

independientemente de que haya momentos en los que no vamos a llegar a acuerdos

y otros espero que sí independientemente de eso no será por la práctica del rodillo porque ante estas cosas que se dicen del rodillo yo sí quisiera decirles algo

es una actitud y creo y creo que no se puede hablar de rodillo en este primer caso que hemos tenido

de legislatura y también creo que los acuerdos sin hacer ningún tipo de escapismo hacia la responsabilidad propia pero dependerán en gran medida en gran medida de ustedes de todos ustedes por lo tanto yo les animo a que bueno hemos creo que hemos comenzado con un buen tono independientemente de que no hayamos llegado

busquemos ese resultado manteniendo el tono en los próximos cuatro años

gaur hona ekartzen nauen kasuan bizitzari buruzko hausnarketa la vida debería ser al revés se debería empezar muriendo y así ese trauma está superado luego te despiertas en una residencia mejorando día a día después te echan de la residencia porque ya estás bien

dice mi madre que también es una grande que de cuidados y de agricultura entiende un poco

y yo creo que aunque es uno de octubre el dicho no caduca y que es tiempo de sembrar pero de sembrar cuidados

se han dado toda la vida y a cada tiempo le toca el suyo llevamos tiempo observando la composición de la tierra

seleccionando semillas seleccionando buenas prácticas en cuidados detectando malas hierbas todo aquello que el sistema no nos ha dejado con lo que el sistema no nos ha dejado prosperar

vemos que el clima es lo suficientemente desfavorable pero a la vez lo suficientemente propicio para que podamos sembrar aquello que queremos recoger en el futuro

la hemeroteca del parlamento me he dado cuenta de que los cuidados se han debatido en varias vertientes en este pleno en forma de mociones de pnl de diversos tipos de iniciativas

a amplios consensos es de reconocer el trabajo que esto supone en grupos parlamentarios distintos

el tema de llegar a consensos y otras que ya no están también y hay que agradecerles

doazen ekintzekin lan egin ahal izateko debemos arraigar nuestra siembra de cuidados tanto en las vidas de las personas como la de nuestra

la siembra como los cuidados necesitan también unas condiciones propicias para que sean justos sanos corresponsables y socialmente equitativos

desde la interdependencia que guardamos con el resto de personas y con la naturaleza y la tierra que habitamos trabajemos desde la puesta en valor de nuestra

la pandemia nos ha obligado a replantearnos las formas de organizar la vida social y particularmente las de organizar el trabajo todos los trabajos los que son remunerados y los que no

que estructuran nuestras sociedades en términos de clase género etnia y estatus migratorio entre otras no podemos dejar de mencionar a las mujeres migradas

tierra abonada de la desigualdad y desde luego

es nuestra prioridad esta legislatura y que va a ser uno de nuestros terrenos de trabajo un terreno que hay que mimar airear proteger para que los frutos sea buenos porque la vida es lo que se cuida

sembrar cuidados para recoger y cultivar para cultivar y recoger cambios es indispensable a pensar y proponer soluciones estructurales a problemas estructurales es indispensable sacar este debate a la superficie y ese es mi objetivo

con el firme propósito de que los cuidados sean reconocidos y valorados social y políticamente y ocupen un lugar central en la agenda de este parlamento esta legislatura y eso hay que hacerlo con una mirada feminista porque es desde el feminismo

birpentsatzeko eskatzen die como dice beatriz cubilledo en un artículo de ayer mismo cuanto más complicado es sostener la vida

por eso es urgente apostar por la justicia en el hogar entendiendo los cuidados como parte del sistema económico los trabajos del hogar son imprescindibles para que la sociedad funcione alcanzar la corresponsabilidad real en las tareas de cuidados en un sentido amplio

los roles de género asociados a la misma es fundamental es fundamental también dar más significado al concepto de trabajo

las reproductivas las tareas que sostienen la vida y promover calidad en todos los trabajos

es fundamental además abordar fórmulas del cuidado desde lo comunitario como bien común como una participación igualitaria de todas las personas

que sirvan para transformar nuestros barrios nuestros pueblos y ciudades y hacerlos espacios de cuidados y es fundamental desde los servicios públicos garantizar cuidados de calidad que acompañen a las personas y les procuren un trato digno

ponemos esta proposición no de ley encima de la mesa instando por un lado a la creación de una ponencia sobre un sistema de cuidados en euskadi que cuente con la participación de expertas de organizaciones sociales y del movimiento feminista

seguir dando respuesta a las urgencias que enfrentan los cuidados todos los días trabajando en el cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados

porque creemos que la ponencia es una de las herramientas parlamentarias más apropiadas para construir unas bases sólidas y consensuadas ante un tema un espacio donde escuchar sosegadamente ponentzia

porque nuestro estado del bienestar se ha construido sobre un inmenso trabajo femenino no reconocido no remunerado o mal remunerado y que con esta crisis ha quedado al descubierto

ha sufrido un progresivo desmantelamiento y privatización de los servicios sociales y ha supuesto una gran precarización del trabajo de las mujeres que desempeñan estos servicios

o las trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio que han sido y son referentes de luchas laborales

y para que puedan garantizar además vidas dignas a las personas que dependen de ellas leía estos días en un artículo que se titulaba conquistar la vejez señalaba bueno en este artículo se señalaba una cuestión que me parece fundamental a la hora de abordar

y cómo el cumplir años es un factor de precarización para la vida de todas las mujeres y de las personas con identidades no binarias

ancianas o niñas pone en peligro su futuro porque la mayoría de los sistemas de seguridad social públicos se calculan en función de los años de trabajo capitalista

sino que además lo hacemos hipotecando también el futuro de miles de mujeres que los proporcionan quién cuida de las que nos cuidan

a la gente joven con dificultades para componer el modelo de familia que quieren

y las personas mayores y las personas dependientes que no tienen la seguridad de que puedan disfrutar de los cuidados adecuados es decir es un modelo viejo

los cuidados tienen que ver con la economía con el medio ambiente con la ecodependencia con los derechos humanos con la justicia social con la solidaridad y sobre todo sobre todo con la igualdad y con las políticas públicas emergencias como las que

y nos obligan también porque es un clamor de la sociedad civil a plantear un nuevo sistema y unas políticas eficaces que protejan a todas las personas y que incorporen

y la interseccionalidad en todas ellas la ponencia

debe servir para poner todo esto encima de una mesa institucional y escuchar a las expertas y consensuar unas bases para transitar hacia un sistema propio de cuidados en euskadi

euskal herritarren eskubide subjektibo gisa aitor ditzaten bizitza osoan zehar por eso desde elkarrekin podemos izquierda unida pensamos que es urgente hacer propuestas de políticas responsables innovadoras frente a la crisis de los cuidados que estamos viviendo

onerako y les invitamos también porque creemos que es desde la cooperación y desde el debate colectivo desde el sosiego donde tenemos que seguir trabajando creo y creemos que esta forma de hacer política esta forma feminista debe convertirse en habitual

genuke votar en contra de esta propuesta sería cerrarnos la oportunidad extraordinaria que tenemos

para echar las semillas de un cambio necesario porque nos va la vida en ello y porque como administración tenemos que ser diligentes con garantizar el derecho público al cuidado y a la igualdad

jarraitzearen pisua atsedenik hartu un apunte en este sentido

recientemente en mayo indica que si el malestar psicológico ha aumentado en todos los grupos considerados en este estudio

significativamente mayor en las mujeres las razones son muchas pero la más destacable

de los servicios y trabajos esenciales para seguir adelante gran parte de ese impacto se debe a que la sociedad las hace responsables de los cuidados en un sentido amplio hay demasiadas mujeres sintiéndose culpables porque no llegan a todo porque el teletrabajo no siempre lleva aparejada una mejora de la conciliación o el derecho al descanso

traemos aquí esta ponencia para todas ellas pero también para todas nosotras

como la recuperación social y emocional de esta pandemia y porque queremos dejar de sentirnos culpables y porque tenemos que sentir que la política es útil fructífera y transformadora es tiempo de sembrar cuidados para recoger cambios y a esto os emplazamos apoyando la creación de esa ponencia eskerrik asko zuen arretagatik

elkar ikustea alguno de los pronunciamientos que hemos alcanzado en este parlamento sobre el tema de cuidados como decía

que haya tenido la deferencia y la atención y que haya empleado parte de su tiempo en

yo creo que todos tenemos que estar orgullosos de la labor que este parlamento y los distintos grupos hicimos en esta materia concreta y a las distintas portavoces como se ha dicho aquí algunas no están

a la labor que en esta materia hicimos y sobre todo que alcanzamos muchos acuerdos importantes

he nombrado mejor dicho en mi enmienda de totalidad porque más allá de la constitución de una ponencia sobre cuidados que ya digo que este tema nosotros creemos que hay que circunscribirlo

en temas mucho más amplios no solo de los cuidados sino el tema de las residencias el tema de la dependencia el tema de los espacios sociosanitarios es decir aquí hay cosas

que están vinculadas que no se pueden separar y obviamente creemos que es mejor hacer un análisis de todas ellas y como decía también tenemos

eh bildu tiene una iniciativa de residencias este grupo tiene otras residencias para que se analice la situación y el modelo de residencias con los déficits que se han detectado en la gestión de toda esta pandemia como decía

son objeto y el contenido de la mitad de transacción que finalmente hemos alcanzado con los grupos que apoyan

a las dos portavoces obviamente también quiero agradecer su generosidad y su visión también de seguir un poco la senda del acuerdo en esta materia

creemos que aquí había que avanzar en esta comunidad autónoma teniendo en cuenta que este es un sector claramente feminizado y había una necesidad

su labor aquí hay que apelar sin duda a la corresponsabilidad a la conciliación el papel

las empresas cuando hablamos de cuidados hablamos de cuidados impartidos por los profesionales

son en domicilios o en centros específicos como pueden ser los centros residenciales y los cuidados en el entorno familiar que también bueno pues generalmente

hay situaciones en las que son prestados por profesionales que se dirigen a estos domicilios

nosotros también criticamos que ese decreto pues adolecía de algunas cuestiones que además se hacía referencia a ellas en algunos informes propios del gobierno vasco

el acuerdo de la revisión del decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve

esto es otro de los puntos que recogíamos en nuestra enmienda

en la enmienda de transacción y en este punto concreto sí se hace referencia a establecer los ratios de personal adecuados diferenciar los distintos niveles de dependencia y las especificidades de las unidades psicogeriátricas y sociosanitarias

se atienda la tipología naturaleza y tamaño de los diferentes centros residenciales

sicogeriátrica la unidad sociosanitaria y la unidad de convivencia otro de los puntos también que hemos acordado y que han sido recogidos

con el espacio sociosanitario y el plan de atención sociosanitaria que acaba la vigencia este año creemos que aquí

que hacer y sobre todo también viendo las deficiencias y los problemas que yo creo que no nos podemos negar que ha habido en la gestión de esta pandemia en las residencias que ha llevado lamentablemente a que el número de fallecidos haya sido ciertamente elevado y también bueno pues el número de personas que han sido contagiadas

elaborara un plan integral de acción para analizar la situación en dignificar las condiciones de la vida de las mujeres pensionistas vascas

una estrategia específica que además se comprometió la consejera en la contestación a una interpelación sobre esta materia una estrategia

no profesionales por lo tanto también se recoge se recogía en nuestra enmienda y en la enmienda de transacción la mejora continua del servicio vasco vasco de servicios sociales recogido en la ley del dos mil ocho

es el colectivo que

prestaciones tipología y qué tipo de dependencia

al que le tenemos que agarrar y cómo no vamos a hacerlo

todas juntas con toda nuestra imaginación con todas nuestras capacidades e invitando a toda ese pensamiento colectivo que hay en estos momentos en marcha

una propuesta más constructiva y más pausada y tranquila y aprovechable que esta en un momento como estos pues

seguiremos trayendo el tema de los cuidados no sé por qué me haces así con la

que me parece una pena de verdad no no le estoy diciendo a usted eso señora sánchez pero me sorprende creo que lo estoy haciendo

decidido no hacerlo que me parece sinceramente y desde lo personal

que de una vez pasemos de una ciudadanía a una cuidadanía

debatimos mucho sobre cuidados y se obtuvieron amplios consensos en todos estos debates y todos los grupos parlamentarios de esta cámara estábamos de acuerdo en la importancia que tienen los cuidados en el desarrollo de nuestra sociedad y además que esos cuidados siguen recayendo todavía mayoritariamente sobre las mujeres por lo que es importante seguir avanzando en la corresponsabilidad de la pareja

de apoyo institucional que pueda ser utilizada por el ciudadano

y a punto de finalizar la anterior legislatura el seis de febrero tuvimos el último debate en este parlamento en materia de cuidados pero en este periodo hemos sufrido la incidencia y los efectos del covid diecinueve el cual ha generado

aún más crudamente esta cuestión y se han adoptado medidas de choque por las instituciones a nivel estatal y autonómico

en euskadi y que han permitido resistir utilizando todos los recursos para ello pero que hay que seguir haciendo a la pandemia y debemos de seguir tomando medidas a futuro es por ello por lo que el acuerdo de gobierno

socialista hemos plasmado los objetivos a seguir siendo el objetivo

público de salud así como la reconstrucción social y económica

para conseguir salir de esta crisis mucho más cohesionados con un estado de bienestar fortalecido y reduciendo desigualdades

y que sigue realizando por eso corresponde ahora adoptar las decisiones

y acelerar las reformas teniendo como base también el trabajo hecho anteriormente en la anterior legislatura pero alineándonos con la agenda dos mil treinta de naciones unidas y todo ello sin dejar a nadie atrás debemos de conseguir con las políticas públicas que se lleven a efecto que la mujer no tenga que renunciar a su carrera profesional

necesarios en sus familias a sus hijos a los mayores a los dependientes y además que una persona dependiente pueda elegir si prefiere quedarse en su entorno habitual con apoyos informales

deben reforzar los programas de apoyo en los cuidados garantizando la calidad de los mismos se están llevando a cabo actuaciones y próximamente va a presentarse la estrategia para personas cuidadoras no profesionales con un enfoque socio sanitario

haber efectuado un proceso participativo con personas mayores y asociaciones del sector para dar un enfoque transformador de los cuidados han sido ellos quienes han querido que esta estrategia se centre en el ámbito no profesional

no profesional sin perder por otro lado la atención al cuidado profesional está llevando a cabo en estos momentos la revisión del decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve y como se acordó ya en la moción

del veinticuatro de octubre del dos mil dieciocho para mejorar los ratios

transaccional firmada entre el grupo nacionalista vasco el grupo socialista y el grupo popular ciudadanos donde se solicita entre otras cosas que se siga trabajando en la modificación de este decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve así como también

recogíamos dentro de los puntos un recordatorio de diferentes mociones

por parte de emakunde de un plan integral de acción para analizar y situar y la situación de la condición de vida de las mujeres pensionistas vascas

dirigidas al reconocimiento del valor social de los cuidados dentro de esta estrategia de personas cuidadoras

profesionales se quiere impulsar un nuevo paradigma con el que poder dar respuesta a una nueva generación de personas cuidadoras

dispuestos a cuidar pero con apoyo sin comprometer su proyecto de vida y reforzando el apoyo formal los servicios de respiro y apoyo a personas cuidadoras

basado en unos principios tiene que ser integral multidimensional incorporar un enfoque innovador

incluye a la propia persona cuidadora como sujeto de derecho la democratización de los cuidados

tener un carácter preventivo y elaborarlo desde un enfoque comunitario y dentro de la enmienda transaccional también se recoge la referencia

o la de siete de marzo del dos mil diecinueve

todavía en estos momentos no han pasado por las comisiones correspondientes los consejeros

y las líneas de actuación de cada uno de los diferentes departamentos es por ello por lo que no estamos de acuerdo

de cuidados la finalidad que pretende conseguir con su creación que es poder aportar

aportaciones así como por patronal y sindicatos se está llevando a cabo se está realizando

de la estrategia y por otro lado se está llevando a cabo y se va a llevar a cabo en la

del decreto ciento veintiséis barra dos mil diecinueve esa oportunidad ya la tienen y la van a tener

por eso consideramos que era importante y hemos apoyado la enmienda transaccional

y el grupo popular ciudadanos porque recoge otros compromisos y recoge también una recopilación de los compromisos que ya acordamos

que estuvieran todos identificados dentro de la misma nada más eskerrik asko sánchez andrea euzko abertzaleak ipiñazar

eta esan du que las familias no pueden esperar baina beste alde batetik esan du no queremos correr

no significa correr significa trabajar para dar respuesta a las personas que verdaderamente

aipatzen duguna ere bai dela la estrategia de personas cuidadoras no profesionales

la estrategia de personas cuidadoras que lleva trabajando el gobierno vasco

un modelo de participación público social de las personas mayores que nace de la estrategia vasca de gobernanza con las personas mayores

en los diez distintos foros de este modelo participativo han tomado parte cuatrocientos personas constituye uno de los pilares de la estrategia vasca de envejecimiento activo

las personas que envejecen en euskadi pueden formar parte de compartir la definición de los problemas que les afectan y colaborar con la administración en la búsqueda

es decir el gobierno vasco sí que ha escuchado a los agentes implicados en los cuidados el objetivo del proceso

preguntar y conocer qué necesitan las personas cuidadoras qué les está faltando qué propuestas de mejora existen

posible las principales conclusiones de esta reflexión colectiva servirán para nutrir la elaboración de estrategia vasca de personas cuidadoras no profesionales que el gobierno vasco se comprometió a presentar en el dos mil veinte y de aquellas necesitadas de cuidados poniendo el acento en la perspectiva de género y en la corresponsabilidad de hombres y mujeres

además esta estrategia incluye las recomendaciones de la comisión europea respecto a los cuidados de estas personas tenemos presentes los objetivos de esta estrategia orientada a asegurar el acceso a servicios de apoyo y de respiro de los cuidadores

desarrollar planes de cuidados personalizados mejorar la atención a las familias a los familiares cuidadores prevenir detectar y abordar situaciones inadecuadas

eta gizarte errekonozimendu formalago eta egokiago bat debemos avanzar en el derecho de ser cuidado y cuidar en un sistema sostenible

facilitar el acceso a recursos de apoyo para contribuir a mejorar y garantizar la calidad de los proyectos vitales y creemos que la mencionada estrategia se centra en ello

esaten zauen tenemos que entender la importancia del cuidado como valor humano fundamental que debe estar en la base misma de la sociedad del futuro

voy a ser muy breve la actual crisis sanitaria ha evidenciado que aún hay mucho trabajo por hacer para tener un buen sistema de cuidados tanto en españa como en el país vasco así que desde vox apoyaremos todas aquellas medidas que permitan avanzar en esta línea

evidencian que ya en la pasada legislatura se adoptaron decisiones tendentes a mejorar el sistema de cuidados en euskadi

tanto las personas cuidadoras como quienes necesitan de sus cuidados esperan de ustedes algo más que acuerdos que no se cumplen necesitan que pongan en su cumplimiento al mismo
al menos el mismo tesón que han puesto para hacer realidad un cordón sanitario en esta cámara contra un partido absolutamente democrático eskerrik asko

cuando les oigo a las representantes

transaccional no puedo menos de pensar

a qué tienen miedo no a qué tienen miedo de apoyar esta ponencia

que recogen en su enmienda nos ofrecimos a recogerla nosotras de hecho o sea hemos tenido un primer borrador

creamos la ponencia pero no por ello vamos a dejar ni vamos a olvidar

los acuerdos derivados de las mociones que se aprobaron y que se aprobaron muchas conjuntas y que

de reconocer porque fueron acuerdos de prácticamente todos los partidos políticos esos acuerdos se tienen que cumplir es que lo que no ha lugar es que

en una enmienda menciona mociones

y aquí estamos hablando de otra cosa estamos hablando de una ponencia a ver y además

pero sobre todo lo más importante el haberlos cumplido

y además cuando hablamos de cuidados hablamos

señora garrido o sea ha mencionado las residencias estamos hablando de muchísimas situaciones más de muchos otros aspectos de la vida que requieren cuidados y que no son solo los que ahora mismo visibilizamos en el hospital en la residencia a los cuidados no profesionales es que hay un montón de cuidados

hoy ni se han mencionado estamos hablando de los que tienen que ver con la tierra con la producción con el primer sector estamos hablando de los cuidados

estamos hablando de los cuidados de cero a tres años no me salen de memoria pero estamos hablando de un montón de aspectos que abarcan los cuidados

que quedaban excluidas antes de esta pandemia de la percepción por ejemplo de la renta de garantía de ingresos

bueno ustedes con su enmienda solicitan dar cumplimiento a acuerdos que ya fueron impulsados o que han sido consecuencia un trabajo previo y

me gusta la voluntad de intentar llegar a acuerdos pero en este caso

un poco defraudada porque yo creo que la ponencia y aquí las personas

contra los abusos sexuales a la infancia ha sido un éxito ha sido un éxito de fórmula se pueden escuchar eskerrik asko

eta beste gauza batzuk en más de una ocasión apelan al trabajo comunitario al auzolana para sacar adelante retos y

no sé si se hace en este formato pero yo les pediría que ahora mismo se replanteen la votación porque

no sé si es que no quieren trabajar con la sociedad civil o con el movimiento feminista o con todas conjuntamente

por qué ahora no por qué en este caso no cuando estamos hablando de un espacio abierto y amplio para debatir sobre un tema que no son solo de verdad

del trabajo de cuidadoras no profesionales es que hablamos de muchísimas otras cosas más sean valientes ahí lo dejo

con ojos de niña pero con juicios muy profundos y además habla de desigualdades y sobre todo de las desigualdades a las que nos enfrentamos las mujeres

para que la vida la empatía y el cuidado mutuo sea

a esta cámara que como usted misma ha reconocido y además ha tenido oportunidad de leer en las múltiples intervenciones que hemos tratado esta cuestión no se trata de miedo se trata de prudencia yo creo que una cuestión como el tema de los

cuidados en muchos ámbitos pero también es decir en una sociedad como la que estamos muy envejecida donde

y requieren unos cuidados específicos y las personas mayores yo creo que podemos hablar de muchos cuidados pero yo principalmente preferiría que cuando hablemos de cuidados hablemos de cuidados a las personas que realmente necesitan cuidados en el ámbito sociosanitario en el ámbito sociosanitario y las personas

vulnerabilidad ha quedado más patente si cabe con esta crisis por lo tanto yo creo que es una cuestión de prudencia no podemos parcelar el tema de los cuidados y desligarlo

de debate en la pasada legislatura sí que es cierto usted también decía es que se repiten y se hace referencia a pronunciamientos y acuerdos de la anterior legislatura

no se han cumplido en ese sentido pues si no se nos han cumplido los acuerdos o están en ello el gobierno pues yo creo que es

el objetivo que perseguía este grupo y es lo que ha conseguido y en ese sentido sí que quiero agradecer pues a los grupos que apoyan el gobierno esta vez sí pues

esa visión de poder avanzar en cuestiones que hablamos la legislatura pasada y que es necesario culminarlas para seguir avanzando y quizás en otro momento pues su cuestión sea una cuestión de más oportunidad es decir en este momento

eserlekutik hitz egiten du sí gracias presidenta bueno yo creo que poner en valor el trabajo

recoger la recopilación de esos acuerdos que adoptamos es importante y

esa participación se está llevando a cabo además ahora mismo entonces miedo a la participación ninguna ustedes han propuesto una posibilidad

la participación se está llevando a cabo están interviniendo en la elaboración de la estrategia como he dicho en mi primera intervención están interviniendo y van a intervenir en la reforma del decreto ciento veintiséis del dos mil diecinueve entonces

no existe tienen vías de participación otra cosa es que podamos estar de acuerdo o no en que sea conveniente la realización de esa ponencia pero miedo a la participación ninguna por eso nosotros hemos

de todos esos acuerdos el incluir la necesidad de realizar esas campañas informativas

avanzar en ese tema y por eso vamos a apoyar la enmienda transaccional firmada entre el grupo nacionalista el grupo socialista y el grupo

no existe porque la participación se está produciendo eskerrik asko sánchez andrea ipiñazar andrea euzko abertzaleak zurea da hitza bertatik

y hablo también desde el corazón en la cabeza como has dicho porque precisamente yo igual

precisamente yo estoy en los dos bandos tengo estoy en el bando de los parlamentarios en el que estamos ahora y por otra parte estoy en el bando de cuidadora también porque tengo a mi ama pues que necesita veinticuatro horas

telegráfico absolutamente breve la semana pasada incluíamos esta proposición no de ley en el orden del día de este pleno en relación con los erte y la preocupación que había ayer se publicaba el real decreto ley de treinta barra dos mil veinte de medidas sociales en defensa del empleo

elemento básico de la actuación económica social laboral en este momento yo

la retirada de la iniciativa que se aborda en este momento existe un acuerdo

entre gobierno patronal ceoe cepyme y los sindicatos que recoge de alguna manera también alguna de las inquietudes que nosotros

en la proposición no puede ser de otra manera los acuerdos se han tomado esta misma semana en algún caso además in extremis

ya en agosto debido a la preocupación del conjunto de la sociedad

de la crisis y las medidas que autónomos que trabajadores que empresarios pues reclamaban y requerían en relación con esta cuestión y una de ellas era esa prórroga

gestión de los erte en relación con el espacio con el tiempo no y con su dimensión

ha habido un acuerdo y esa preocupación y esa inquietud bueno que se ha mantenido hasta el límite hasta ayer mismo que se publicaba día treinta de septiembre pues ahí estaba hemos leído

cómo se va desarrollando dice muchas cuestiones aborda elementos importantes iremos viendo cómo se desarrolla esa prórroga y

en los distintos sectores que eso también veremos y que analizaremos haremos ese análisis

en este momento y después de esta aprobación con los sectores sociales económicos de este país

oír a la consejera de empleo de trabajo en relación con cómo se va a dinamizar todo eso y qué perspectivas va a tener en este momento en este país en euskadi en ese sentido presentábamos esa inquietud en agosto la hemos mantenido hasta hoy mismo ayer

el decreto ahora nos toca el análisis el ver y el contrastarlo con los agentes económicos y sociales por eso anuncio la retirada de la iniciativa muchas gracias

para no aburrirles y para que no se alargue su jornada pero bueno creo que este acuerdo se alcanzó hace un par de noches creo que el partido popular ha tenido tiempo de habernos

que la retiraban y sobre todo pues creo que una vez intervenido el señor barrio

intervenir brevemente todos los grupos y sí que quería decir

tres cosas más o menos breve porque creemos señor barrio

a otras cámaras autonómicas en otros territorios y también creo que a otras instituciones y ayuntamientos creo que lo han hecho durante

de su estrategia de oposición y derribo al gobierno de españa y en particular a la ministra de trabajo porque sabían perfectamente que se estaban negociando estas medidas que se estaba hablando en

y sindicatos en el famoso diálogo social al que tantas veces se aluden incluso su grupo

que cuando traemos determinadas iniciativas nos estamos inmiscuyendo en el diálogo social y ustedes durante estas semanas

patronal y ministerio de trabajo pues no han hecho otra cosa que precisamente inmiscuirse y poner

de ese acoso al ministerio de trabajo porque ustedes a veces

sobre el diálogo social cuando en este país todo el mundo sabe que el principal partido

cuando ha gobernado y en este tipo de materias pues ha legislado

sin necesidad de acuerdos en materia de diálogo social y en concreto la última reforma laboral es

de esa política y de esa actitud en cualquier caso a nosotros nos parece que es una cuestionable estrategia por su parte porque

traía al parlamento vasco una petición pidiéndole al gobierno de españa que haga lo que el gobierno de españa ya ha hecho por lo tanto

que ustedes la retiren y simplemente una alusión porque entre las iniciativas que se han presentado

en casi todos los grupos pero había una propuesta en concreto

que yo creo que no la hubiéramos aceptado nadie y que me parece una indecencia absoluta que pretenden y están pretendiendo también a raíz de esta iniciativa en otras instituciones

no tengan que recibir indemnización por despido por parte de las empresas y que sea el estado

del modelo que tenemos y de las herramientas que ya existen para cuando una empresa realmente no pudiera pagar

ante este panorama los erte han sido un instrumento que ha servido

para sostener el empleo en el primer impacto de la covid e impedir que como en la anterior crisis la primera medida a tomar sean los despidos aunque hay que decirlo también

reducidos sus salarios en esta proposición no de ley es el pp quien pide que se prorroguen y amplían los erte a pesar de que bueno ya como sabemos todos y todas

pero en su iniciativa además nos dice que este instrumento fue incorporado a nuestra legislación en la última reforma laboral nada más lejos de la verdad los erte han venido formando parte de la legislación laboral me atrevo a decir casi desde los inicios de la vigencia del estatuto de los trabajadores

en regulación se decía entonces pero quizás el desconocimiento del pp sobre los erte tiene que ver con el hecho

que es lo que verdaderamente promociona su reforma laboral porque no está de más recordar cuestiones que el pp incorporó en la reforma laboral

a través de reformular las causas a las que las empresas pueden acogerse para justificar los despidos

que consiste en poder justificar los despidos no solo por las pérdidas actuales de la empresa sino también en la posibilidad de tenerlas

no solo a las dificultades económicas y o productivas de la empresa sino al hecho de disminuir los beneficios o las ventas respecto de un ejercicio anterior

eliminaron el control de los ere por parte de las consejerías de empleo de los gobiernos autonómicos y a falta de acuerdo entre empresa y representación sindical hoy la última palabra la tiene la empresa en su caso queda por cuenta de los y las trabajadoras corregir los posibles abusos en un control judicial

porque casi hicieron innecesario que los empresarios tuvieran que sentarse en una mesa

ya están incluidas en la reforma laboral redujeron la prestación por desempleo bajando del sesenta por ciento al cincuenta por ciento de la base a partir del sexto mes siguiente el propio acuerdo

a remediar los recortes del gobierno del pp planteando el mantenimiento de la prestación de desempleo en un setenta por ciento pasados los primeros seis meses

si como se viene o venimos diciendo esta crisis no puede volver a caer la en la espalda de los y las de siempre

a nadie atrás está claro que no se puede gestionar esta crisis con los mismos instrumentos con los que se gestionó la anterior

no hemos escuchado pero hemos escuchado en otros momentos decir que la soberanía que solicitar que exigir que reivindicar la soberanía para nuestra comunidad no tiene nada que ver con los intereses de la gente pero hoy en este parlamento si contáramos con la capacidad competencial en

el debate de su prórroga de a qué sectores económicos deben extenderse en qué condiciones para los trabajadores y trabajadoras y hasta qué plazos de tiempo lo hubiéramos hecho aquí en atención a nuestra realidad

y escuchando las demandas de los agentes sindicales y socioeconómicos vascos y en este caso además incluyendo la posición del partido popular a la vista de las posiciones de los grupos parlamentarios de la sesión de hoy
o saldríamos con la decisión tomada sin esperar a que otros decidan por este parlamento mila esker eskerrik asko garcía andrea

bueno hoy en este punto es curioso porque estamos asistiendo a una situación un poco excepcional

se retira un punto se retira antes de empezar a debatir y ya está pues porque han cambiado las circunstancias porque ya se ha cumplido lo que se pide

en la iniciativa original etcétera pero el señor barrio hoy nos dice que la retira pero nos trae al debate cosa tan completamente

porque en realidad se ha retirado yo le voy a decir unas cuantas cosas señor carmelo

a haber esta primero me sorprendió que lo presentaran ustedes pero una vez presentada

se retirará se retirará porque es lógico si se estaba viendo hace muchos días

que efectivamente se ha adoptado pero además me sorprende porque el otro día en el debate que tuvimos su compañero de grupo el señor

manifestó que votaba en contra de esa iniciativa porque argumentaba que

consideraba que impedir o dificultar a las empresas regular su plantilla ajustar las necesidades del mercado

pues a lo mejor mejor porque así se mantenían más tiempo

su compañero de grupo diciendo y además pedían en su propuesta que no solamente se ampliaran hasta el treinta y uno de diciembre sino que además sino hasta marzo y bueno primero pónganse ustedes de acuerdo dentro del grupo porque desde luego lo que dijo el otro día

no tiene nada que ver con lo que ustedes han planteado hoy aquí porque son completamente

las dos posturas y por otro lado el partido popular no ha hecho nada más que poner

para que en el ámbito europeo se dificultara al máximo el acuerdo para poder conseguir el mayor número de recursos precisamente para destinarlos

pues una incongruencia también absoluta entre las políticas que ustedes hacen a nivel estatal y lo que nos han planteado desde luego hoy aquí

a nivel estatal que cambiaran un poco también sus políticas

sentido y se adaptaran a que las cosas que plantean aquí sería bueno porque desde luego me parece más coherente cuestiones como la que ha puesto aunque ya desde luego se veía venir que no iban a ser necesarios y estoy de acuerdo con la señora garcía en lo que acaba de decir que desde luego ustedes no crearon los erte los erte han existido lo que pasa es que antes existían expedientes de regulación de empleo de suspensión y de extinción

y ere pero ustedes también introdujeron en su reforma del año dos mil doce

unas correcciones que ahora mismo si no se hubieran corregido dentro

muy perjudiciales para los trabajadores en muy poco tiempo porque

introdujeron la reducción del porcentaje de la base reguladora que va a percibir la persona trabajadora transcurridos seis meses desde la aplicación de los erte los erte que ya empiezan y que ya

aplicándose desde hace tiempo podían empezar los trabajadores a sufrir esa modificación al cincuenta por ciento que ustedes metieron en su reforma y que no existía

y ese perjuicio se corrige en el acuerdo porque se establece que no se producirá esa reducción en ningún caso con lo cual los trabajadores tienen cubierto ese setenta por ciento de la base reguladora que garantiza prácticamente la totalidad de sus salarios

este tercer acuerdo social de defensa del empleo adoptado dentro del ámbito

social entre el gobierno de españa la patronal y los sindicatos comisiones y

hasta el treinta y uno de enero pero que lo amplia no solamente introduciendo

muchas más posibilidades amplía sectores

que mejoran aún más el acuerdo que existía

porque la enmienda ha sido retirada pero desde luego mejoran bastante y también quiero poner en valor

que se la exposición que se acaba de presentar por parte del lehendakari de la vicelehendakari y consejera de trabajo y empleo

mendia y de la consejera de desarrollo económico sostenibilidad y medio ambiente arantza

que presentaron esta semana el programa de reactivación económica y empleo en euskadi y que además dentro de ese programa se introduce la posibilidad seguir aplicando los complementos

es decir teniendo en cuenta la mejora que se ha producido en el acuerdo estatal y teniendo en cuenta que aquí tenemos garantizados los complementos evidentemente el perjuicio que el mantenimiento de los trabajadores que tengan que seguir incluidos dentro de los será muchísimo menor desde luego no he entendido que mantenga el

la posibilidad de presentarle lo que pienso pues desde luego ya le he dicho lo que pensaba

lehendakari sailburuak legebiltzarkideok eguerdi on denoi yo por respeto a todas y a todos

me sorprende señor barrio me sorprende

nos somete a un pequeño mitin recoge los bártulos y sale por la puerta de atrás sin someterse a votación

muy poco elegante me parece muy poco elegante y no le reconozco no le reconozco

detrás de ese punto hay trabajo hay trabajo de muchas personas

no le reconozco con lo cual hoy estamos por lo visto hablando de una de estas necesidades a las que hay que dar respuesta el empleo en concreto el mantenimiento del mismo y como respuesta a ello una concreta figura los erte

de que a futuro cuando recordemos esta situación que estamos viviendo que hoy estamos viviendo haremos referencia a ella como la era la época de la pandemia y también estoy seguro que en el ámbito laboral la recordaremos recordaremos esta época como la época de los erte un símil

congelar una empresa bien yo siempre he tenido

más de sedación diría así de sedación farmacológica

entiendo la empresa como un organismo una realidad viva en la que a veces hay tensiones lesiones dolores y puede ser conveniente destensar relajar

si leemos con detenimiento el artículo cuarenta y siete del estatuto de los trabajadores dentro de la sección tercero referida a la suspensión del contrato

volviendo al símil si utilizo un procedimiento de congelación muy traumático congelo o

hay un punto de congelación al contrario con la sedación puedo desde sedar levemente un dedo un pie un ojo hasta aplicar una anestesia total en el organismo

es decir nos permite aplicar medidas con más o menos intensidad y además nos permite aplicarlas de forma más o menos focalizadas así es esta figura jurídica a mi juicio se puede por tanto reducir la presión que ataca a esa empresa aplicando la medida más ajustada la medida más proporcionada a esa presión y manteniendo el organismo en todo momento vivo las constantes vitales se mantienen incluso en ese coma inducido yo siempre he entendido esta figura así

pero siempre la he entendido así y cuando digo siempre me refiero desde mil novecientos ochenta y cinco que es la primera vez que leí un manual de derecho del trabajo por eso señor barrio

y le cito un instrumento incorporado a la legislación en la última reforma laboral ya lo han comentado la señora garcía y la señora sánchez a ver

que creasen la figura y están repitiendo mucho esa falsedad dos veces ya el segundo afeamiento dos veces en un día esto es inaudito para mí referido a usted de hecho

hasta la actual crisis el momento pico de utilización de la figura como también ha comentado la señora garcía ese momento pico es mil novecientos ochenta y tres con ciento veintitrés mil personas en erte yo me acuerdo bien

en dos mil trece en dos mil trece después de su reforma laboral en la que hace referencia en su justificación con seis coma dos millónes de personas desempleadas

muy buena reforma no hicieron muy buena reforma no hicieron a mí así me lo parece si hubiesen querido hacer una buena reforma habrían atendido a otros como nosotros que planteábamos otros modelos hacíamos otros planteamientos de figuras jurídicas

planteamientos nuevos creatividad jurídica para modificar por ejemplo cuestiones como el cuarenta y siete dos la reducción de la jornada de trabajo

para que sea una solución operativa que nos ayude eficazmente en esta situación necesitamos además de la figura jurídica que sobre esta cuestión como decía habría mucho que hablar

el acuerdo los recursos gure zuzenketa

errekonozimendu bat da baina argazki bat besterik ez porque no es suficiente una fotografía

no es suficiente un concreto acierto está bien que haya un acierto en un momento clave pero no nos podemos conformar con eso de acuerdo

reconozco aciertos pero tener política de empleo no es igual a haber acertado una vez ni dos

tiene su calado sin duda no como el instrumento cuya paternidad

yo estoy seguro de que si los erte se hubiesen utilizado de manera

el ajuste de plantilla no habría afectado a tantas personas trabajadoras pero también estoy seguro de que la destrucción de empleo habría sido mayor

fotos buenas que se conviertan en largas secuencias que articulen una auténtica política de empleo y suele ser muy difícil conseguir muchas secuencias de buenas fotos si no se planifica una estrategia de cómo vamos a hacerlo

por ello a mi juicio lo importante de nuestro texto de enmienda son los siguientes los dos puntos siguientes el tercero y cuarto

y también la autoexigencia la exigencia al gobierno vasco de avanzar en esa política de empleo en ese sentido de exigencia quiero recoger dos ideas que desarrolló nuestro diputado el señor barandiaran

una primera idea necesitamos certezas y seguridad para recuperar el mercado laboral segunda idea necesitamos aprovechar

y todas sabemos que es caduco tenemos que acertar

y esto es un objetivo que debe ser compartido ese día dieciséis con el señor barandiaran yo creo que

para exigir y autoexigirse ayer mismo también nuestro portavoz en el congreso el señor esteban hablaba de estas

hay que apostar por lo que pueda transformar el pasado veintitrés de septiembre miércoles firmábamos y registrábamos el texto de la enmienda que hoy defiendo en el tercer punto defendíamos el diálogo social como vía para seguir

acordando las medidas más eficaces y seis días después tenemos esas prórrogas de las

con salarios más bajos acogidas a la figura

un claro ejemplo de autoexigencia de este gobierno en el cuarto punto

en que diseñe una nueva estrategia por el empleo y la reactivación seis días después antesdeayer teníamos al gobierno vasco con el lehendakari a la cabeza presentando el programa para la reactivación económica y el empleo trece mil doscientos cincuenta millónes de euros por todo esto yo defenderé mi texto

nos han permitido responder en un momento clave a una situación de excepcionalidad pero esta figura necesita de otras sobre todo necesita de una buena política de empleo como la que está diseñando el gobierno vasco como les decía

para la reactivación económica y el empleo este es el camino respuestas de choque y realistas para combatir la situación económica

solo caminando todos en la misma dirección podremos afrontar mejor los retos que tenemos ya por delante y en especial el gran reto económico tenemos un objetivo compartido trabajemos y acordemos